ya es hora como decía de que veintiséis años después la actual ley de protección de los animales de euskadi que data de mil novecientos noventa y tres se adecúe realidad social y a la nueva realidad jurídica de la euskadi del siglo veintiuno una realidad social que rechaza el maltrato

y que rechaza el sacrificio de aquellos animales que han sido abandonados una nueva realidad jurídica en la cual

que a día de hoy se encuentran en una situación de alegalidad y nuevos hábitos y costumbres de la sociedad vasca que cada vez convive

con sus propios animales de compañía hay que decir que la ley

no fue una mala ley incluso fue una ley adelantada a su tiempo por eso en la modificación que presentamos hoy que la presentamos como una ley nueva pero en el fondo mantiene la estructura la misma estructura la misma sencillez

el mismo reparto competencial entre ayuntamientos diputaciones y gobierno vasco sin embargo creemos que la ley la modificación de la ley que presentamos hoy es un avance sustancial es un avance

se extiende a todos aquellos animales domésticos que conviven con el ser humano a los animales de compañía por supuesto pero también a otros animales domésticos

exóticos que hoy en día también se utilizan como animales de compañía sin embargo no todos los animales están incluidos de aplicación de esta ley por qué porque existen normativas sectoriales que les afectan existen normativas sectoriales que en algunos casos también se encargan

bienestar por lo tanto en esta ley hemos excluido tanto lo referente a la caza como a la pesca como a la fauna silvestre que se encuentra en el medio natural y a los espectáculos

también quedan excluidos aquellos animales llamados de producción o renta es decir aquellos relacionados con la ganadería o con las granjas a día de hoy sin embargo sin embargo creemos que esta

no le resta efectividad a la ley porque a día de hoy a día de hoy las cuestiones fundamentales como el maltrato el abandono sobre todo el sacrificio

en nuestra ley bastante más afinadas de lo que lo estaban en la ley del noventa y tres y como digo bastante más adaptadas a los nuevos tiempos hasieran aipatu dut tratu txarrak

voy a terminar porque no voy a agotar el turno de defensa de la ley no me voy a en sus contenidos porque los contenidos están abiertos esta ley desde el principio nuestro grupo la proponía como un proceso abierto un proceso consensuado con todos los grupos parlamentarios desde el primer momento así se lo hicimos saber a todos los grupos políticos y tengo que agradecer tengo que agradecer a los grupos que soportan al gobierno porque en la medida en que esta ley no entraba dentro del calendario legislativo del gobierno

asumieron o admitieron que nuestro grupo pudiera trabajar en ella pero especialmente quiero agradecer la predisposición del grupo eh bildu porque

estando en la oposición sino que además incluso nos ha hecho llegar antes de la propia presentación enmiendas y aportaciones que entendían importantes el contenido

de varias personas algunas relacionadas con asociaciones de protección de los animales otras no que han hecho una labor desinteresada y altruista en la cual solo les ha movido el cariño

en sí mismo ya es un valor supremo en nuestra sociedad del siglo veintiuno pero nuestro grupo en la tramitación también ha mantenido el pacto

de ahí que hayamos tardado más de año y medio en registrarla y otro medio año en traerla aquí a la consideración de la cámara nuestra idea es

sacar del debate aquellas cuestiones que pudieran resultar en un momento dado más polémicas porque entendemos que si el consenso social en torno a esta materia es grande

el consenso político que genere agradecemos desde aquí al gobierno vasco el criterio favorable que nos ha dado un criterio favorable condicionado a que diéramos audiencia

eudel y el propio gobierno vasco tengo que decirles aquí que a todas esas administraciones nos hemos dirigido y con todas ellas a día de hoy nos hemos reunido ya ha habido varias reuniones y ya tenemos algunas de las aportaciones que tienen

aun así y no estando obligados como no lo estamos por ser un grupo de la oposición y por ser esto una proposición de ley también abrimos después del registro un trámite de mejoras al cual pudieron participar diversos colectivos sociales que se sentían

y hemos identificado más de cuarenta puntos de mejora sobre el texto que ustedes hoy van a poder votar termino diciendo que

a una sociedad vasca moderna y sensible como es la de este siglo veintiuno no solo buscamos hacer la mejor ley posible con la colaboración de todos y todas no solo buscamos el consenso social y político con esta ley

avanzadas en materia de protección y bienestar de los animales y para ello sin duda necesitamos el apoyo de esta cámara para continuar la tramitación eskerrik asko

gracias señora presidenta señor lehendakari consejeros señorías desde el grupo popular hemos votado a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley porque coincide en gran medida con la propuesta por el grupo popular hace más de un año un año que

aprovechado para hacer un texto y hoy podría estar aprobado

dotarnos en la comunidad autónoma vasca de un instrumento jurídico actualizado eficaz y garantista en la defensa y en la protección de los animales de compañía insisto en lo de animales de compañía porque es lo que han aprobado todos ustedes en navarra exactamente

integral y decía que ambos textos si bien se diferencian

aquellos aspectos no contenidos o insuficientemente contemplados

como por ejemplo puede ser las obligaciones de poseedores titulares o responsables de animales y la identificación de animales las condiciones de transporte de animales del comercio de los animales lo relativo a la protección de los animales extraviados y de los centros de recogida de los mismos los requisitos los plazos

también los requisitos y condiciones que deben reunir los centros y establecimientos de alojamiento para el cuidado de los animales tanto con carácter general como específico en los establecimientos de cría de venta y en los de adiestramiento

efectivamente esta proposición contiene una novedad la creación de un consejo vasco de la convivencia y protección de los animales es curioso que algo que sea novedad no

en cualquier caso quiero decir que es curioso también que aquellos que venían o decían llegar a la política para ser el pronto la bayeta mágica

a la primera de cambio eso sí como siempre que se crea algo que no se sabe muy bien para qué va a ser su composición y funcionamiento se reglamentará a posteriori no

en el capítulo de régimen sancionador coincidimos prácticamente en lo referente a inspección infracción y sanciones sí que en el importe de las sanciones

significativamente las cuantías y tiene aspectos de mejora

esencial incluirla solo en el título tres se habla de exclusiones y aquí las

pero si vamos a exclusiones tampoco se definen porque no hablan de animales sino de actividades actividades que ya tienen su normativa la caza la pesca los espectáculos

no se hace referencia a los animales y a esto el gobierno en su respuesta no hace ninguna referencia resulta más integral así

eso que usted ha llamado señor becerra dejar la ley abierta

como les decía tengo un amplio margen tenemos un amplio margen de mejora del texto propuesto y trataremos de contribuir con nuestras aportaciones a mejorarlo no puedo pasar por alto el criterio del gobierno y sus motivaciones en esta legislatura el gobierno lo está dando todo en sus criterios y motivaciones a las proposiciones de ley

que dan para un estudio profundo la iniciativa propuesta habla de las competencias municipales y

no incluye ningún nada nosotros sí que incluíamos en nuestra propuesta

profundamente en un sitio dice usted se ha pasado y en otro no están no entendemos a la propuesta que nos ocupa dice en su artículo quedan prohibidos los espectáculos y actividades que incluyan la presencia de animales así como las atracciones feriales tipo carruseles y otros animales

que no aborda problemas en nuestra comunidad autónoma revistan de

no aborda en la medida que aborda determinados problemas que no se dan en euskadi

o carruseles quiero decir que de verdad el criterio del gobierno podría haber sido mucho más concreto más acorde a la realidad

en dos tomas de consideración que abordan textos muy similares por lo tanto

actitud va a ser de colaborar de incorporar aquellas

iniciativa y que suponemos y creemos que mejoran

la proposición de ley que hoy nos ocupa eskerrik asko lópez de ocariz andrea euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

la idea de esta proposición de ley tiene su arranque en el inicio de la legislatura ya lo ha señalado también el señor becerra entonces estuvimos a favor de esta

incluso estuvimos dispuestos a presentarla conjuntamente luego bueno pues la evolución nos ha llevado hasta este tiempo

de ley y por supuesto que estamos a favor la protección y bienestar de los animales también es una responsabilidad de los poderes públicos y por lo tanto lo es

presente proposición de ley da un salto cualitativo sobre nuestra ley de los años noventa desde entonces muchas administraciones europeas de españa

han ido avanzando en esta dirección y los socialistas queremos mejorar ese espacio de protección animal en una mejor y más efectiva protección jurídica pero como estamos tratando de los animales pues ahora hablaré

porque como nos enseñan a diario nuestros compañeros perfectos casi nunca tienen menos de cuatro patas porque son buenos amigos no hacen preguntas no critican

que muchos humanos quisieran para sí porque son grandes comunicadores ya que su idioma es universal

hay que escucharle por la lección de vida que nos dan a quienes comemos sin tener hambre bebemos sin tener sed

por la gran inteligencia que poseen gracias a la cual no necesitan acumular patrimonio comprar coche teléfono o pedir créditos porque cuando mueren no necesitan ir al cielo queremos una mejor y más efectiva protección jurídica para que el hombre deje de ser el rey de los animales gracias a su brutalidad

porque quien es cruel con los animales no puede ser buena persona porque comparto la afirmación

una parte del alma sigue sin despertar también

un animal filosófico tenaz en sus propios hábitos aficionado al orden y la pulcritud desinclinado hacia el sentimentalismo extravagante que te ofrece su amistad y rechaza tu esclavitud

que son cuatro gatos con los que comparto tiempo afecto

la conciencia de protección se extiende basándose en el respeto a los derechos de los animales a unos niveles que eran impensables hace unos años gure ondorengoentzat gure seme alabentzat

y los máximos responsables de este cambio han sido las numerosas asociaciones en defensa de los derechos de los animales que trabajan a diario en euskal herria

porque ellos ellas fueron los primeros en hablar de derechos de los animales y son ellos y ellas quienes siguen trabajando a diario a pie de calle en los centros de protección animal en hogares de acogida etcétera

como ya hiciera anteriormente la ordenanza aprobada en el ayuntamiento de gasteiz de protección de los animales en colaboración con las asociaciones en defensa del derecho animal

prohibición de prácticas inadecuadas como mutilaciones con fines estéticos

que la adecuación de las sanciones a unas cantidades acordes a la gravedad de las posibles infracciones probablemente ayudará a que las cosas vayan cambiando

legebiltzarkideok egun on guztioi tenemos en este país una ley de protección de animales del año noventa y tres por cierto los últimos tiempos que se viene hablando de la nueva legislación he oído hablar muy bien de que era avanzada para su tiempo y moderna

de que era retrógrada de que se había quedado corta pero en este país ya estamos acostumbrados a que cuando terminas una carrera

ese es otro tema como iba diciendo tenemos una ley de protección de animales han pasado veintiséis años

en otras pues desgraciadamente no pero en esa materia ha cambiado mucho y por tanto todo el mundo nos vamos poniendo de acuerdo en que hay que cambiar la legislación hay que adaptarla y esa nueva legislación en cualquier caso solo va a tener un fallo

que en la relación entre el ser humano y los animales domésticos

porque por desgracia todavía los perros y los gatos no tienen capacidad

que va a tener inicialmente esta ley en cualquier caso nosotros nuestro grupo desde el primer momento se planteó que

de basarse en dos patas fundamentales una la aportación de las organizaciones que se dedican a la protección de los animales son la punta de lanza social

sobre la nueva relación que se tiene que tener con los animales domésticos y aunque no necesariamente supongan la media de la opinión social sí entendemos que su filosofía su visión tiene que plasmarse en la ley y la otra pata es que esa

una ley de estas características va a tener seguro una gran carga de trabajo en las administraciones y las administraciones tienen que dar su visión realista de qué

esas nuevas materias nos consta que la ley elkarrekin podemos el anteproyecto de ley que ha trabajado tiene la visión de las organizaciones proteccionistas yo creo que hoy han venido a aquí para ratificar que es así

que se ha trabajado con las administraciones que van a gestionar fundamentalmente con las diputaciones forales que son las que más carga de trabajo van a tener con esta ley por tanto nuestro sí es un sí a un anteproyecto de ley que nos consta que viene trabajada con organizaciones protectoras de animales de euskadi trabajada con las administraciones de euskadi y además

de seguir negociando a lo largo de la tramitación de la ley

nuestra garantía es que vamos a trabajar intensamente en lo que quede de negociación para avanzar en la ley y sobre todo

hablamos de un amplio grupo de personas que crece de manera notable que se encuentran en una situación

y que proporcionalmente es bastante mayor que el que presenta el euskadi y es lo que representa la euskadi quebrada una

necesariamente matiza ese dato inicial del ochenta y cinco por ciento

incluida porque revela cómo están viviendo las personas el proceso de recuperación económica y la están viviendo con un nivel de precariedad vital brutal eso es lo que reflejan los datos

hasta el punto de que les voy a contar una anécdota que me pasó después de la interpelación que realizamos

en un nuevo ejercicio de negacionismo el departamento de empleo subió un twitt señalando y subrayando que

acompañarle a la consejera en terminar esa frase y le acompañé los datos

la foto completa y casualmente casualmente tuve un me gusta bastante poco esperado y era del propio departamento de empleo con lo cual yo creo que eso evidencia que estamos ante una realidad que es

ez dugu ikusi y los presupuestos presentados por el departamento

claro de lo que hay no son un indicador claro que esta realidad descrita por la encuesta del epds y ratificada después por foessa

a los recortes recortes y miren seguramente el no querer llamar a las cosas por su nombre ha impedido que hoy de manera inexplicable no tengamos un acuerdo

podemos quizá lo ocurrido hoy sea el primer ejemplo o la primera escenificación

lo que limitan esos acuerdos las acciones y el poder desarrollar aquello que se dice o el poder hacer aquello que se quiere hacer

de garantía de ingresos según la consejera porque la recuperación económica ha permitido que las personas salgan del sistema de prestaciones porque tienen otras posibilidades

hacen que esa lectura sea simplista y sea tan simple que solo sirva para justificar

en inversión social no hay respuestas por ejemplo para las situaciones de precariedad vital o el empeoramiento de las situaciones de las mujeres que aparecen en esos datos

ni tampoco para esas mujeres pensionistas que como supimos ayer son las que sufren la mayor brecha de género no tampoco en el ámbito de nuestras competencias eh porque ni siquiera se propone

esa campaña que acordamos hace ya dos años para que todas esas personas que son pensionistas que tienen derecho a la prestación de la renta de garantía de ingresos pero que no acceden por diferentes motivos

tampoco tenemos hecho y tampoco tenemos una respuesta por ejemplo a las familias a las familias con hijos que sabemos que es donde se acumulan las situaciones o tampoco a las situaciones de pobreza energética que sabemos que nos sitúan a la cabeza no solo de europa sino del estado no hay apuestas en materia de protección y además ni siquiera con ese acuerdo presupuestario alcanzado con elkarrekin podemos

podemos que no tienen dotación presupuestaria que entiendo que al ser crédito ampliable lo incluyen ahí la realidad es que pese a eso

va a ser menor al que se realizó en el dos mil diecinueve y va a ser la menor

seis años yo creo que eso es bastante elocuente y luego todos los cambios se remiten a la reforma una reforma con la que yo creo que ya todas y todos deberíamos ser honestos

la protección o la visión estrategia sobre estratégica sobre la protección dependen en este país de lo que vaya a venir de la reforma

tampoco hay una apuesta por el desarrollo de la ley de servicios sociales se ve con claridad en el ámbito

ni tampoco en el empleo tampoco en el empleo pese a que los datos en este sentido son brutales cien mil personas que no llegan a fin de mes pese a estar currando personas un veinte por ciento de los perceptores de renta de garantía de ingresos son trabajadores un ocho por ciento de los trabajadores están en situación de pobreza yo creo que es más que evidente cuál es la situación no y tampoco esta situación se ha visto revertida

lo que me enseñó mi compañero mikel otero que recién venido de méjico yo creo que viene al caso no estamos ante la misma situación si la cosa va bien

la cuestión es que ya no nos vamos a quedar como estamos la cuestión es que vamos para atrás y estamos perdiendo posiciones a marchas forzadas y los indicadores

jardunaldietara gonbidatzen dituzten horiek gomendatu bezala datorrela viene de la aplicación de las políticas de salarios mínimos que por cierto es una recomendación que hace la oit siguiendo

los objetivos de desarrollo sostenible que hablan de reducir amaitzen joan bai

las tasas de desigualdad de los países sobre todo haciendo hincapié en los ingresos de aquellas personas

por eso tiempo ya de que pongamos en marcha políticas de salarios mínimos herri honek mila berrehuneko gutxieneko soldataren aldeko apustua egitea

hoy en día porque es verdaderamente grave que

la población en situación de pobreza grave sea un sesenta y cuatro coma nueve por ciento superior respecto a la de dos mil ocho y las personas en situación de pobreza relativa un veinte coma dos por ciento superior y ante esto creemos que no cabe otra cosa que actuar actuar para mejorar

en tres pasos indispensables en primer lugar hay que dar respuestas inmediatas a las personas que peor lo están pasando hay personas que necesitan resolver necesidades básicas de su vida cotidiana y ahí tienen que estar las instituciones y en ello nos reafirmamos en nuestro compromiso para eliminar los recortes que la renta de garantía de ingresos sufre desde el año dos mil once y esa estaremos siempre desde elkarrekin podemos pasito a pasito

es nuestro horizonte en segundo lugar hay que tener en cuenta que dar respuestas a la urgencia es absolutamente compatible con la búsqueda de mejoras estructurales profundas para ello y tal y como añadimos en nuestra enmienda entendemos que por un lado

la retirada de la proposición de ley para la reforma de la renta de garantía de ingresos y por otro lado consideramos necesario reformar la ley dieciocho barra dos mil ocho para la garantía de ingresos y para la inclusión social en aras de que avance en materia de protección social

de una manera más justa más garantista y con perspectiva de género y esto debería hacerse una vez que ya hemos escuchado a las personas expertas en el parlamento

un proyecto de ley con los informes pertinentes e incluyendo los elementos comunes de la gran mayoría de esas personas expertas así consideramos

en primer lugar avanzar hacia la individualización de la renta de garantía de ingresos incluyendo la perspectiva de género en segundo lugar facilitar la gestión de la renta de garantía de ingresos y en tercer lugar reducir las condicionalidades de la misma y como tercer paso hay que entender

al inmediato y al corto plazo es necesario hacia transformaciones y mejoras estructurales y profundas debemos tener en cuenta la existencia de necesidades prácticas y de necesidades

las primeras hacen referencia a lo material e inmediato las segundas a las transformaciones de los pilares de la desigualdad y desde elkarrekin podemos

desde que llegamos a esta institución de forma constante y firme para dar respuestas inmediatas y también para abrir camino a las transformaciones por ello nuestro horizonte sigue siendo y seguirá siendo el de apostar por garantizar la existencia material de toda la ciudadanía de euskadi y lo hemos dicho y por pasiva hacen falta transformaciones profundas no valen las soluciones de siempre porque los sistemas de rentas mínimas garantizadas tienen agujeros y por ellos se está cayendo la gente decía

que debemos explorar sistemas que garanticen y profundicen en el derecho universal a la protección

no podemos seguir defendiendo un sistema

a gran parte de la población necesitada o que si la atiende lo hace percibiéndola como diferente y ese es uno de los retos que tenemos como sociedad porque tan importante como el reto

como el de la consecución de un futuro digno para nuestra juventud o el de la igualdad entre mujeres y hombres es el reto de garantizar una vida digna a toda la ciudadanía

con una crisis económica a la vuelta de la esquina es cuando la política y los acuerdos son más necesarios que nunca este martes leía en el periódico

para el año dos mil veinte para facilitar los presupuestos del año dos mil veinte

y dar soluciones concretas a la ciudadanía hay que traducir las buenas intenciones en propuestas concretas arremangarse para dialogar entre diferentes negociar y conseguir buenos acuerdos para la gente qué pasaría si todos los partidos políticos nos quedamos en nuestro rincón atrincherados en las palabras y las expresiones de deseo sería muy sencillo se hubieran prorrogado los presupuestos pactados con el partido popular para el año dos mil dieciocho

de un mísero uno coma cinco por ciento y ante esta injusticia elkarrekin podemos decidió mojarse y ponerse a trabajar para tratar

que se las ven crudas para llegar a fin de mes y qué ha conseguido

respecto a nuestro sistema de protección social básicamente a mí me gustaría hacer hincapié en dos medidas que creo que entroncan a la perfección con lo que hoy debatimos la primera que además del tres coma cinco por ciento de subida

hemos conseguido que para dos mil veinte la subida interanual vaya a ser de un siete coma sesenta y cuatro por ciento y la segunda es que se ha conseguido garantizar

que quienes en un futuro hubieran podido ser perceptores de la prestación complementaria de vivienda queden sin derecho a percibir la prestación económica de vivienda y somos conscientes de que aún queda mucho camino por recorrer

con estos incrementos pero también somos conscientes de que las personas que actualmente acceden a nuestro sistema de garantía de ingresos en dos mil veinte estarán

y estarán en una situación mejor porque es de justicia

porque solo mojándose se consigue hacer política que beneficie a la gran mayoría de vascos y vascas eskerrik asko

gracias presidenta vamos a debatir una moción consecuencia de interpelación planteada por el grupo eh bildu relativa al retroceso que se está dando en la comunidad autónoma vasca en cohesión social

otra moción muy similar presentada por el grupo elkarrekin podemos referente a la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía vasca

son iniciativas muy similares traídas a esta cámara con tan solo mes y medio de diferencia

a copiarse las iniciativas y repetirlas con muy pocas variantes en la iniciativa planteada

en los datos incluidos en la encuesta epds

de la población en inclusión plena en la comunidad autónoma vasca es del ochenta y cinco por ciento habiendo aumentado veinte puntos entre los años dos mil trece y dos mil dieciocho es decir en los últimos cinco años

y la tasa de exclusión social en euskadi sigue siendo de las más reducidas del estado aunque apenas se ha reducido en estos últimos años

pero a pesar de estos datos se ha producido una pérdida comparativa de ingresos en los grupos de población de menor renta

el crecimiento de la población más desfavorecida y eso a pesar de que en nuestra comunidad autónoma vasca se interviene por encima del resto de las comunidades autónomas

un treinta y cinco por ciento más que la media del estado y este riesgo de exclusión social se eleva entre hogares con hijos familias numerosas y monoparentales

jóvenes personas desempleadas o inmigrantes y por ello tenemos que seguir luchando para evitar la cronificación en la exclusión severa y para que la integración siga aumentando contamos con el cuarto plan de inclusión

en coordinación con diputaciones y ayuntamientos y las entidades del tercer sector por supuesto que hay que seguir trabajando en mejorar y avanzar en protección en nuestra comunidad

y porque queremos seguir mejorando hemos iniciado una reforma de la ley de garantía de ingresos y para la inclusión y precisamente dentro de la proposición de ley que se encuentra en estos momentos en esta cámara tal como han reconocido numerosos comparecientes se beneficia más en cuantía

monoparentales víctimas de violencia de género en concreto a colectivos con más riesgo de sufrir exclusión social y exclusión severa

pero a pesar de que hace un año en junio del dos mil dieciocho se solicitaba por el grupo eh bildu y por el grupo popular poder seguir negociando sin embargo

realizó una propuesta que facilitara dicho acercamiento y conseguir un acuerdo tenemos también medidas para paliar la pobreza energética

ultimado para finales del dos mil dieciocho como se quería porque esas cuantías podían estar

desde hace un año por otra parte se dan pasos importantes dentro de los presupuestos para conseguir un reforzamiento de las políticas de inserción laboral en la renta de garantía de ingresos etcétera en el pleno del treinta y uno de octubre se aprobó

y dado que esta iniciativa era muy similar a la presentada en el pleno del treinta y uno de octubre

socialista propusimos una enmienda a la totalidad similar igual a la que habíamos presentado en esa iniciativa y por tanto nosotros consideramos

que queremos defender en este pleno esta enmienda a la totalidad que hemos presentado entre el grupo nacionalistas vascos y el grupo socialista y en la que se instaba al gobierno vasco

desplegando y desarrollando el sistema vasco de servicios

también se instaba al gobierno vasco a que desarrolle las políticas de inclusión social desde una perspectiva intersectorial y con una articulación interdepartamental

por la tramitación parlamentaria de la proposición sobre garantía de ingresos no hemos intentado enmienda transaccional con el grupo eh bildu porque nosotros consideramos que el presupuesto del año

no es correcto afirmar que no se apuesta por políticas de protección porque sí se apuesta por esas políticas de protección dentro del presupuesto del año

y tampoco estábamos de acuerdo en el abono de un salario de mil doscientos euros en todas las contrataciones con dinero público sin contar

según sector y convenio vamos a avanzar en los próximos meses probablemente en negociaciones para mejorar el salario mínimo interprofesional

en conjunto para toda la ciudadanía pero no estamos de acuerdo en hacer medidas para unos colectivos sí y para otros no sino para todo el mundo

elkarrekin podemos que ha solicitado la retirada de la proposición de ley de la renta de garantía de ingresos porque creemos que no debemos seguir perdiendo

una transacción con el grupo elkarrekin podemos lo que hay que hacer es que ustedes presenten las enmiendas una vez que ya hemos concluido las comparecencias dentro de la comisión de empleo y políticas sociales y podamos debatir y enriquecer el texto con las aportaciones presentadas para que todas esas mejoras

la ciudadanía cuanto antes el grupo popular no ha presentado enmienda pero espero que no apoye las enmiendas presentadas ni por el grupo eh bildu

nosotros como he dicho junto con el grupo nacionalista vasco vamos a apoyar nuestra enmienda a la totalidad nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea

geruzak badaude el ochenta y cinco por ciento de la población de la comunidad autónoma de euskadi goza de inclusión plena la inclusión ha mejorado considerablemente entre los años dos mil trece dos mil dieciocho siendo que los porcentajes de integración plena han crecido en veinte puntos porcentuales así la tarea la tasa precaria de inclusión social ha bajado del cuarenta y cuatro al veintiocho por ciento y los niveles de exclusión han bajado del diecisiete al quince

consolidar y mantener un sistema productivo competitivo en un marco globalizado y al mismo tiempo inclusivo que genere niveles reducidos de pobreza y desigualdad y recursos suficientes para financiar el modelo de protección social ze hemen

neurriak al dira alternatiba en cuanto a podemos sencillamente una cosa lo que piden realmente es la retirada de la proposición de ley para la garantía de ingresos considerando necesario reformar la actual ley de garantía de ingresos en aras de que avance en materia de protección social y permite hacer frente a las nuevas realidades del siglo veintiuno bueno yo creo señor bollain que un poco se lo dice usted todo porque realmente

no tenemos ninguna intención de retirar la proposición de ley precisamente porque nuestra intención es reformar la ley actual en aras de que avance en materia de protección social

a las nuevas realidades del siglo veintiuno y estamos dispuestos a compartir reflexiones con todos los grupos por supuesto que también con ustedes

absolutamente abiertos para con quienes puedan tener interés en avanzar en esa vía

muchas gracias señora presidenta señorías miembros del gobierno buenos días a todos vivimos tiempos de bonanza económica vivimos tiempos de crecimiento de la actividad económica en esta comunidad

de crecimiento de recaudación y nos encontramos en estos momentos tramitando unos presupuestos que

impositiva y por lo tanto un aumento del gasto y la inversión por parte de la administración pública vasca eso según el gobierno se debe a una notable mejoría de la actividad económica otros tenemos la opinión de que se debe en realidad

lo cierto es que dinero hay y ese dinero se emplea en muchas cosas y la actividad económica es importante pero cuando analizamos determinados datos como el que hoy nos ha puesto encima de la mesa la señora kortajarena se evidencia

dentro de la comunidad que está sufriendo más de lo que sufría antes luego que esa abundancia del que dispone el gobierno no está siendo lo suficientemente bien empleado por no decir que no se está empleando para lo que debería hacerse

en la lucha contra la pobreza y la exclusión social no se están cumpliendo a mí sinceramente me da exactamente igual que se cumplan o no los objetivos del gobierno dicho sea con todo

unos objetivos pobres unos objetivos poco ambiciosos lo que no se consigue es tapar la realidad social que nos está rodeando poco a los datos de la encuesta de población como han dicho todos los portavoces que han intervenido ya en este asunto hay algunos que puede que sí y hay algunos que puede que no podemos ponernos a discutir sobre datos yo voy a dar exclusivamente uno aquellas personas que se encuentran en una situación de pobreza grave se han incrementado

perdón los últimos datos que tenemos son la encuesta de pobreza del año dos mil dieciocho se han incrementado las situaciones que las personas

desde el dos mil dieciséis en algo más de un cinco por ciento pero si nos atenemos a los datos del último decenio

si miramos a la cara a esas ciento nueve mil setecientos treinta y cinco personas estarán conmigo

es lo de menos le puede preocupar al gobierno pero no le preocupa a la sociedad por qué

desmesuradamente luego algo está fallando o las políticas no se están llevando a cabo como dice el gobierno que se llevan a cabo o las políticas que se hacen son las correctas o una mezcla de las dos situaciones sorprendentemente tanto los grupos de la oposición como los del gobierno

o han centrado sus discursos en torno a la modificación de la renta de garantía de ingresos nosotros creemos que esa no es la situación al problema

que están percibiendo por encontrarse en la situación económica y social en la que se encuentran lo que entendemos nosotros es que hay que sacar a esas personas

a esas personas hay que darles otras opciones diferentes básicamente tendremos que entrar lógicamente

de trabajo no a aumentarles la cuantía que mensualmente van a percibir a través de la renta de garantía de ingresos la solución tampoco creo que sea que desde la administración pública

netos mensuales por catorce pagas que tanto elkarrekin podemos como eh bildu pide en múltiples iniciativas y me gustaría ser didáctico y voy a poner un ejemplo muy claro hay muchas empresas en la comunidad autónoma de euskadi que tanto para el sector privado como para el público partamos de la base que esas empresas intentan mejorar la vida de sus trabajadores porque lógicamente

como empresa y si trabajan para los dos sectores se van a encontrar con que aquellas contratas para las que dependan de las administraciones públicas van a tener que pagar una más elevada que lógicamente se va a detraer de los servicios que presten para empresas privadas o para el sector privado en general a qué nos llevaría eso

en las contratas que dependan de la administración pública generaremos mayores bolsas de pobreza para aquellos trabajadores que dentro de la misma empresa presten sus servicios para

no me parece la más adecuada generar las condiciones económicas ilegales para elevar ahí el salario mínimo interprofesional que es un objetivo que creo que

en la época económica y en la coyuntura en la que nos estamos moviendo en este momento sería lo positivo pero desde luego no con medidas como esa a través de

las condiciones económicas de todos aquellos que desde el ámbito privado presten su trabajo a través de las contratas públicas

aquí la ensalada de opiniones es completamente distinta bildu dice que no está bien la situación de los presupuestos elkarrekin podemos nos dice que todo está muy bien porque ellos han mejorado sustancialmente los presupuestos

pero al mismo tiempo piden que se retire el proyecto de ley perdón la proposición de ley que presentaron los grupos socialista y nacionalistas vascos

un nuevo proyecto de ley y yo le voy a desvelar ahora que no nos escucha nadie señor bollain un secreto esa proposición de ley aunque usted piense que fueron parlamentarios de los grupos que nos acompañan y que sustentan al gobierno lo que

y elaboraron esa proposición de ley que trajeron al parlamento para intentar modificar la ley del año dos mil ocho no fue así

actuación que yo diría que hasta puede rayar la irregularidad o la ilegalidad ese proyecto venía del gobierno

etcétera lo que hizo fue pasar ese borrador que estaba sin terminar un producto mal hecho y nos lo trajo a la luego la solución señor bollain no es devolvérselo al que los grupos se

a finalizar ese proyecto y traerlo a la cámara dentro de esta legislatura y nos vamos a volver a ver el año en la próxima legislatura o se van a volver a ver en la próxima legislatura debatiendo

con quién quiere modificar la ley nos han dicho que los grupos de la oposición no han dado pasos para llegar a un acuerdo eso es simplemente mentira eso no es verdad

y para sacarla adelante dentro de esta legislatura y creo que todavía estamos a tiempo lo que pasa es que el gobierno señora artolazabal tiene que elegir porque no podemos intentar sacar entre todos una nueva política fiscal cuando estos señores dicen hay que subir los impuestos

hay que bajarlos ustedes no dicen nada y sus socios de gobierno pues en un sitio una cosa y en otro sitio otra se tiene que elegir no se puede

la pelota está en el tejado del gobierno y por ese motivo porque no entendemos que el debate sea

solución a esos problemas y desde luego tampoco imponer desde el gobierno

unas condiciones económicas para los trabajadores que trabajen desde la empresa privada para las administraciones públicas vaya a mejorar la situación de estas

la encuesta de pobreza vamos a votar en contra de las tres posiciones que se han defendido desde esta tribuna muchas gracias

cómo habéis tragado con asumida además ese discurso de

realista de mejoras en relación a la renta de garantía de ingresos aquí hay una ley

ustedes han defendido que marca que marca cuáles son las referencias de la renta de garantía de ingresos todo lo que se sale de ahí son recortes

decía el señor ruiz arbulo lo de proyecto proposición gobierno grupos parlamentarios no y es que precisamente al señor urrutia también se le ha olvidado

que hay un punto que dice el parlamento vasco insta al gobierno vasco a presentar un proyecto de ley con los informes pertinentes

entonces a usted se le ha olvidado nombrar eso y señor ruiz de arbulo nosotros también en nuestra

hablaba de coherencia también creo que en primer lugar debemos preguntarnos por qué estamos hablando ahora de cómo retirar la reforma

no porque todo lo viene porque euskal herria bildu en junio del año dos mil dieciocho

de euskadi que retirasen del debate la propuesta cuando ustedes estaban intentando negociar los presupuestos

y ahí en junio de dos mil dieciocho se perdió una oportunidad

y a pesar de sus esfuerzos por negociarla con el gobierno el gobierno decidió acercarse al partido popular

para que esta reforma pasase a trámite

están intentando salvar los muebles dando manotazos de ahogado y proponen un artículo que nunca antes se ha utilizado

trabajando siempre para hacer oposición a través de los procedimientos

escogen y luego decía usted y estamos totalmente de acuerdo

como elkarrekin podemos y los colectivos sociales aspiramos a la aplicación de la ley y sin recortes pero nos gustaría saber también qué medidas proponen ustedes para alcanzar ese objetivo porque he estado revisando todo el trabajo

durante esta legislatura estos tres largos años y no he encontrado ninguna iniciativa suya o de su grupo con medidas concretas para lograr la eliminación de dichos recortes y es verdad que en prensa lo he leído muchas veces pero propuestas parlamentarias no he sido capaz de encontrar

tres proposiciones de ley que usted también hacía referencia anteriormente ninguna aprobada relativa

relativa a realizar una campaña de sensibilización un código de comunicación y sobre mujeres pensionistas y también

la primera propuesta con la que su grupo parlamentario intentó sin éxito alcanzar un acuerdo presupuestario el año pasado con el gobierno vasco esa propuesta

sabes cuántas veces aparece aquí el término

cuántas veces aparece renta de garantía de ingresos cero según avanzaba la negociación dijeron en los medios que solicitaban revertir

un año después ese recorte ha sido revertido gracias a elkarrekin podemos

en once meses haciendo política de forma responsable

hemos logrado una subida del siete coma sesenta y cuatro por ciento interanual y esto supone que las personas o las familias que no pueden encender la calefacción que no pueden comer carne o pescado dos veces por semana o tienen dificultades para el alquiler en dos mil veinte tendrán cincuenta euros más que lo que tenían hace apenas once meses

que no se acordaron de la rgi ni siquiera en su propuesta de máximos

los presupuestos del año pasado con el gobierno vasco hablen ahora en medios de comunicación de vender humo en definitiva elkarrekin podemos siempre ha defendido y siempre defenderá con uñas y dientes el sistema de protección social

más igualitaria más cohesionada y democrática y por eso mismo ante la llegada de otra crisis

por delante elegimos arremangarnos y mojarnos

declaraciones y expresiones de deseo y hemos entendido que en este tiempo de inestabilidad y bloqueos que nos ha tocado lo más responsable es avanzar

de la trinchera donde todos y todas estamos muy a gusto y muy cómodas al acuerdo entre diferentes

mejorar pasito a pasito la vida de la ciudadanía de euskadi eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

señor bollain mi grupo parlamentario los socialistas vascos también hemos defendido

estamos desde el principio comprometidos con ello y vamos a seguir comprometidos con ello en eso no le quepa la menor duda lo que está claro es que las consecuencias de la precarización laboral sufrida

y eso es una evidencia gracias a nuestro sistema de garantía de ingresos un sistema que no solamente establece unas cantidades para aquellos

un trabajo sino que también complementa esos salarios bajos y complementa esas pensiones bajas y eso ha conseguido paliar

exclusión social en nuestra comunidad autónoma vasca y la exclusión severa lo reconocía hace poco dentro de la comisión de empleo y políticas sociales y lo afirmaba la señora de la rica no existe esa oportunidad en otras comunidades autónomas y además también tenemos que seguir avanzando estoy de acuerdo con usted señor ruiz de arbulo en la inclusión laboral y en ello también se incide dentro de la proposición de la modificación de la renta de garantía de ingresos y para

inclusión hay que seguir luchando para seguir consiguiendo aumentar y mejorar en la inclusión plena y también reducir las cifras de exclusión social y fundamentalmente cómo no las de exclusión severa señor ruiz de arbulo nosotros estamos de acuerdo en seguir mejorando el salario mínimo interprofesional

ha conseguido aprobar el avance en el salario mínimo interprofesional más grande de toda su historia y vamos a seguir en esa línea

en que no se puede hacer a cachitos para unos sí para otros no sino que esas reformas tienen que hacerse en conjunto y global para todos los ciudadanos para evitar distorsiones que se pueden producir también dentro del mercado laboral al intentar favorecer algunos colectivos puedes

a otros y señor ruiz de arbulo hacemos referencia a la renta de garantía de ingresos porque dentro de las propuestas que se han efectuado dentro de esta iniciativa

entonces obviamente el hacer referencia a ello es que es obligado es que nosotros hemos presentado eso como he indicado en mi primera intervención y no es cierta la afirmación que ha hecho usted

hacer los informes correspondientes eso no es la verdad y lo sabe usted se hizo con la intención de poderlo separar el debate

en este año y la forma de poderlo hacer era presentarlo vía proposición de ley se ha dicho no es la primera vez que se dice eso no es un

y se ha afirmado por nosotros por activa y por pasiva desde el principio no se consiguió el efecto que

no se pudo llegar a un acuerdo pero tampoco es cierto que ustedes presentaran una propuesta por escrito ustedes preguntaron dudas en ningún momento hicieron una propuesta por escrito porque yo participé

negociación sí es cierto que se presentó esa propuesta por el grupo eh bildu y una propuesta por el grupo elkarrekin podemos

llegar a ningún acuerdo el grupo elkarrekin podemos aparcó también es una realidad esa negociación porque se centró

ni para los presupuestos del dos mil diecinueve ni para la renta de garantía de ingresos esa es la realidad de lo que pasó entonces vamos a ser serios y vamos a decir aquí las cosas como son y cómo se han producido en toda esta

y estamos aquí estamos en esta cámara y lo que tenemos que seguir es con la proposición de ley en esta cámara para no seguir perdiendo el tiempo como he dicho en mi primera intervención

consideremos pertinentes todos los grupos para mejorar el texto que se ha presentado como se hace en el resto

con el máximo consenso que esa ley sea la mejor posible para todos los ciudadanos nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea

eskerrik asko batzorde legebiltzarburu andrea señor ruiz de arbulo solamente le voy a dar un dato desde dos mil quince más de trece mil personas han dejado de percibir la rgi porque han encontrado un empleo porque

sabiendo sabiendo de que los problemas que hay incluso con la obtención de un empleo y siendo conscientes de la realidad que vivimos

pero ese es el dato señor bollain

que si usted me pide que yo retire la proposición de ley y no tengo ninguna intención de hacerlo por consecuencia lo más probable

que me parece muy bien eso que usted proponía y en los términos que lo hacía pero es que lo uno llevaba

hacer ningún comentario sobre el tercer punto de su enmienda

me ha alegrado oírle cosas como hay que pasar de la trinchera al acuerdo entre diferentes

estoy estamos absolutamente de acuerdo y sepa usted que

estamos en la misma línea también en lo concerniente a la reforma

es decir nosotros estamos dispuestos a pasar de la trinchera al acuerdo entre diferentes lo digo para que

en su conocimiento kortajarena andrea

debemos vivir en mundos paralelos porque usted dice que a las reuniones a las que hemos tenido

para tratar de mejorarla nosotros nunca hemos presentado una propuesta escrita y que por eso yo no he dicho la verdad y debo corregirle señora sánchez mire en dos cuestiones

múltiples reuniones no una múltiples reuniones desde mi grupo para la reforma de la renta de garantía de ingresos reuniones a las que no ha asistido usted nunca pero tampoco

miembros del grupo parlamentario proponente de la proposición de ley

el gobierno insisto no una muchas y han sido reuniones de explicación de aproximación de apertura de conversaciones de entender qué es lo que estaban proponiendo me dice usted que no

podría coger la agenda y darle las fechas y las personas que asistían a esas reuniones nunca se nos ha pedido un papel

dónde queríamos movernos y a dónde queríamos llegar y dónde estábamos dispuestos a apoyar al gobierno para sacar adelante esa ley

el gobierno debe elegir qué es lo que quiere hacer si quiere dejar esa ley

si quiere dar cumplimiento al calendario legislativo que por cierto en el calendario legislativo del gobierno ya se sabía que iba a haber muchos

en su calendario que iba a ser un proyecto de ley y luego cambió de idea y entonces fue una proposición de ley y yo le vuelvo a insistir eso se hizo para evitar todos los informes que conlleva la tramitación de esa

porque la técnica jurídica se emplea en la redacción de ese proyecto de ley no hubiera pasado todos los filtros y los informes por ejemplo de impacto económico

y en esas condiciones hubiera sido muy difícil sacar adelante ese proyecto de ley con el apoyo de elkarrekin podemos o de eh bildu que ahora ya

si hay que modificar la ley o no hay que modificar la ley señora sánchez yo lo único que le digo es que me parece muy triste

la respuesta que le dé este parlamento sea simplemente vamos a modificar la renta de garantía ingresos no

vamos a ofrecerle una mejora de la situación de su vida no a través de la rgi

de la manera que lo hacen el resto de las familias en euskadi yo creo que ese es el mensaje que tenemos que trasladar a esas personas y cuando desde los grupos que apoyan al gobierno lo que se dice en su enmienda es que vamos a seguir haciendo vamos a continuar haciendo creo que se está dando una imagen penosa porque si hemos pasado en hace diez años de sesenta y seis mil personas en esa situación a que haya ciento nueve

se lanza desde el gobierno es que vamos a conseguir vamos a continuar y lo vamos a seguir haciendo y además vamos a modificar la renta de garantía de ingresos si yo me encontrara entre esas ciento nueve mil personas

unas posibilidades de salir de la situación de pobreza grave que es la situación en la que se encuentran según la encuesta realizada por el propio gobierno muchas gracias

hace quince días en el último pleno de control interpelábamos desde el grupo popular

sobre la eficacia y eficiencia sobre el criterio que tenía sobre la eficacia y eficiencia de las labores de investigación que se vienen realizando desde la ertzaintza incidíamos en dos situaciones concretas una

y otra la mejora de los medios materiales que tienen a su disposición nos dijo la señora consejera en una de sus respuestas que efectivamente la investigación era una de los ejes fundamentales de la actuación de la ertzaintza y podemos compartirlo y estamos de acuerdo y nosotros estamos completamente de acuerdo con usted señora consejera en que

en el desarrollo de sus funciones y en la consecución de los objetivos que no son otros que la protección de los derechos y de la seguridad de los ciudadanos

colectivo de grandes profesionales es muy amplio habrá de todo evidentemente pero nosotros sí que estamos con la gran mayoría de los buenos profesionales que integran

ese colectivo esté bien dirigido y usted nos decía el otro día que la formación era buena que era suficiente y que en los últimos años se habían formado a cuatrocientos

investigación criminal también nos daba el dato de que uno de cada cuatro agentes de la ertzaintza se dedicaba a la investigación lo que nos lleva a pensar si hacemos una regla matemática rápida

dedicados a la investigación si solamente se ha formado a cuatrocientos sesenta y dos la formación debe ser o no alcanza a todos los agentes que son necesarios y nosotros le proponíamos una serie de medidas para la mejora

incidamos y nos dejó bien claro algo que yo desconocía en que era necesario activar el expediente electrónico que pusiera en contacto a las oficinas a los juzgados de instrucción y a las fiscalías y a los a diferentes

del departamento de justicia con los de la policía autónoma para que evitáramos tener que ver a los agentes portando preparando en papel esos atestados llevando esos atestados a los juzgados portándolos bajo el brazo que era un gasto absolutamente insostenible y sobre todo

y de efectivos humanos porque si eso se hiciera a través de una empresa de mensajería pues esos agentes se podrían dedicar a otra cosa si se puede enviar por correo electrónico directamente o dentro de la propia aplicación evitaremos que esos agentes pierdan horas durante el día y eso llevará

las labores que se llevan a cabo desde las comisarías mejoren sustancialmente porque la realidad señora consejera es que siete de cada diez delitos de los que tiene conocimiento la ertzaintza se quedan

no tienen respuesta alguna de cara al ciudadano siete de cada diez ciudadanos que se atreven a ir a una comisaría a poner en conocimiento de la policía que han sido víctimas de un delito

a esos autores de esos posibles delitos que los ciudadanos ponen en conocimiento de la policía y esos expedientes nunca llegan al juzgado y por supuesto como no se tiene

por los jueces y tribunales y por supuesto los ciudadanos nunca obtendrán ningún tipo de gratificación

que medidas como las que ustedes toman en ciertas comisarias céntricas de bilbao no son las más adecuadas y me estoy refiriendo a esos carteles que decoran las

entra y ve si ha sido usted víctima de un robo de un móvil de un bolso

que es lo que le va a tocar esperar aquí porque efectivamente no hay medios humanos suficientes para atender a los ciudadanos o espera esa larga cola y si no quiere esperar la larga cola ponga la denuncia oiga utilice un formulario de estos de multicopia y me la deja en el mostrador o si no lo que puede hacer es pedir una cita previa que hoy hay mucha gente mañana también habrá mucha gente pero ya le daremos una cita previa para que usted vuelva

desde el departamento como la tasa de resolución de delitos es muy alta y aquí no contamos los delitos que se cometen en la calle sino los delitos de los que tiene conocimiento la ertzaintza vamos a evitar que la ertzaintza conozca tantos

digamos a desanimar a que los ciudadanos pongan en conocimiento de la policía la comisión delitos cuando son víctimas de delitos de los denominados leves

con la documentación las llaves el teléfono móvil o simplemente un teléfono móvil no es un delito leve porque un teléfono móvil en la mayoría de los casos es un ordenador donde la vida personal y profesional de las personas está ahí metida y queda en manos de un tercero y eso supone un grave quebranto

que a uno le quiten las llaves de su casa junto con la documentación para que alguien pueda entrar en su casa no es un delito leve y que cuando llegue a comisaría se encuentre con un cartelito de

no funciona dentro de la organización de las comisarías que usted

mejore el expediente electrónico y usted nos dijo claramente que no era cosa suya que ustedes los deberes los tienen hechos y que es un problema

la señora consejera no ha podido venir y eso que esta moción va dirigida no solamente a usted señora beltran de heredia y precisamente gracias a sus explicaciones hemos extendido esa petición que queremos realizar hoy desde esta tribuna a que también sea la consejería de justicia quien lleve a cabo todas las labores necesarias porque creemos que la pelota está en su tejado

poner en marcha ese sistema de expediente electrónico que comunique comisarías con fiscalía y con juzgados e incluso en el título de la iniciativa se dice que sean también otros departamentos del gobierno vasco porque si estuviera la señora san josé aquí saldría a la tribuna y nos diría que no es culpa de ella que en realidad la culpa es del señor erkoreka o de ejie y que son los de servicios informáticos e irían pasándose el balón caliente

no conseguiríamos que en dos mil veinte se ponga en marcha nosotros solamente le hemos fíjese que somos generosos en el plazo un año en un año pongan en marcha

que se mejore la formación de los agentes la formación

el proceso penal señora beltran de heredia es muy sencillo el proceso penal tiene una serie de claves tenemos una ley de enjuiciamiento antigua pero perfectamente estructurada

no está perfectamente estructurada para usted bueno bien es su opinión

los jueces y los fiscales a la hora de ejercer sus funciones

claro de cómo funciona esa ley a la hora de instruir el atestado saben perfectamente en qué puntos tienen que incidir y esa formación no se puede dar a uno de cada cuatro agentes dedicados a la investigación hay que dársela a todos

y la investigación especial de determinados delitos quizá no la deban recibir todos los agentes quizá hay que tener a grupos de agentes muy especializados en un asunto muy especializados en la persecución de delitos económicos ya sé que tenemos una unidad

que por mucho que se dediquen y estuvieran allí veinticuatro horas al día metidos no darían abasto para

altamente complejos delitos medioambientales

y usted tenía el apoyo en álava de la unidad de la patrulla verde de los miñones y les dieron una patada y ahora prácticamente no salen a ejercer sus funciones lejos de mejorarlo

otros tantos delitos que son afortunadamente pequeños en número pero complejos en su resolución

muy muy específica y por eso le pedimos a través de esta iniciativa que yo creo que es

de poner en práctica que a lo largo de dos mil veinte y en cumplimiento de la propia ley de policía vasca

la formación en ambos casos para todos los agentes en unos casos y para agentes específicos dedicados a la persecución de delitos muy específicos y muy concretos y que necesitan de una preparación más especial esos son los objetivos que hoy le pedimos a usted señora beltran de heredia y me dirijo a usted también a las señora san josé y al señor erkoreka responsable

se ponga en marcha el sistema de expediente electrónico lo antes posible dentro del plazo de un año y las labores de formación que hemos detectado que todos conocemos y estamos de acuerdo en que no son las mejores que se pueden mejorar como usted reconoció en la interpelación del otro día
y por eso solicitamos el apoyo al resto de los grupos muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

egun on denoi eskerrik asko mahaiburu andrea hoy nos toca debatir en torno a una moción que nos acaba de presentar el señor arbulo

para empezar quiero incidir en la reflexión en torno al modelo de seguridad que es la base fundamental a la hora de establecer qué tipo de policía queremos tener para nuestro grupo parlamentario como ya hemos manifestado en multitud de ocasiones y como ya desarrollamos más en profundidad

de la ley de policía la definición de seguridad dentro de las políticas del departamento

se centra en el concepto de seguridad ciudadana y criminalidad

que nosotras proponemos la seguridad humana

de necesidad es un concepto amplio que contempla un abanico de amenazas

y contra el bienestar de las personas en comparación con la diversidad de amenazas que contempla la seguridad humana la seguridad ciudadana resulta un concepto mucho más

la seguridad ciudadana puede entenderse como una modalidad específica de la propia seguridad humana relacionada con la seguridad personal y más específicamente con amenazas

nos encontramos ante un modelo policial que debería responder a las necesidades reales del ámbito policial ya que la mayor parte de las intervenciones de la policía son de tipo asistencial muy por encima de actuaciones concretas relacionadas con la represión o con los delitos

y promulgamos se asienta sobre una formación de la misma diversa multidisciplinar completa integral y normalizada que las personas que la reciben puedan recibir toda la formación necesaria en las diferentes áreas y materias y por supuesto que se compatibilice con el propio desarrollo de sus vidas hace ya unas semanas debatimos

en relación a que esta formación se impartiera en espacios suficientemente

necesario y que las personas aspirantes no perdieran el contacto con la realidad y con el día a día además de tener en cuenta la conciliación con sus vidas personales de cada aspirante y nos parecía importante porque el modelo policial ha de asentarse para nuestro grupo parlamentario

preparada consciente y conocedora y esto es muy importante del entorno social

capaz y formada ante nuevas realidades existentes que vulneran los derechos humanos

que no realice en ningún caso actuaciones desproporcionadas ante la defensa de los puestos de trabajo de las trabajadoras como ocurrió hace un mes en la empresa

y como así lo denunciamos en esta cámara una ertzaintza que proteja

el derecho de huelga y el derecho al trabajo derechos que están siendo amenazados y hay que recordar que su vulneración es delito una ertzaintza que esté preparada e intervenga ante los delitos económicos

es un abuso de poder público para obtener una ventaja y legítima en beneficio privado una constante para obtener decisiones favorables de quienes ostentan el poder una ertzaintza que actúe en defensa del derecho a la vivienda

no es en ningún caso el espíritu recogido por la quinta modificación de la ley de policía de este pasado junio que se aprobó con el apoyo del grupo que hoy nos trae la iniciativa señor arbulo

que no responde a la necesidad de un cambio hacia un modelo de seguridad humana y por ende hacia un modelo policial cuyo eje central sea la garantía de derechos

de toda la ciudadanía y consideramos que a todas luces la iniciativa que hoy nos ha traído para debatir y que ha presentado el grupo popular vuelve a traer medidas que van

una enmienda a la totalidad que constaba de dos puntos instando al departamento de seguridad y al departamento de trabajo y justicia del gobierno vasco a incorporar

específicos relacionados con un mayor conocimiento técnico de todos los tipos delictivos especialmente los relacionados con los delitos laborales

el derecho a la huelga y la salud laboral los delitos económicos y los delitos de corrupción y además que se incorporara en los informes anuales que

la relación de las actuaciones que se derivaban de todos los tipos de delictivos abordados así como de las denuncias

en relación a ellos de alguna manera su enmienda como ya le digo nos parece que sigue la misma línea de las últimas iniciativas que ustedes han presentado y de un debate que ya tuvimos hace unos meses

que nosotras defendemos y por ello apostaremos y votaremos en favor evidentemente de nuestra enmienda
y no abstendremos ante la suya mila esker eskerrik asko garcía andrea euskal sozialistak

presidenta señorías escuchando

se pudiera deducir que euskadi es un país inseguro que la policía autónoma es poco eficaz que los delitos quedan sin investigar

que la justicia actúa escasamente sobre los delitos que no hay coordinación en el gobierno en las tareas que necesariamente tiene que ser compartidas me gustaría saber sobre qué trabajo

se traen opiniones particulares opiniones muy parciales

y situaciones mayoritarias y la realidad no es esa los datos así lo avalan los datos contrastados no dicen o no apuntan

tiene sensación de seguridad solo un porcentaje muy pequeño de la ciudadanía sitúa la inseguridad como un problema lo que sale en muestras sociológicas es un cuatro por ciento

es altísimo que es lo que realmente preocupa y genera inseguridad a la mayoría de la ciudadanía cuando esto sucede el veinticinco por ciento de la ertzaintza se dedica a través de investigación policial policía judicial o inteligencia

las diligencias por vía de urgencia son altas si se comparan con otras administraciones la relación con las autoridades judiciales y con la fiscalía es constante una relación que llega a que jueces y fiscales participen

situar en todo caso los problemas en la dimensión que tienen y no en una dimensión inventada abultada

etcétera el señor ruiz de arbulo con su iniciativa nos pide que en el dos mil veinte sea operativo el expediente electrónico

con la administración de justicia y nos pide que mejoremos la formación que se mejore la formación

nosotros estamos de acuerdo con ambos planteamientos queremos la conexión electrónica de los expedientes con esta moción y sin ella porque estamos trabajando en eso queremos mejorar la formación porque la mejora de la formación es una actividad continua no es una mejora puntual es una mejora continua y la estamos haciendo con esta moción y sin ella quizás el mayor choque pudiera darse

conexión con el resto de las policías cuando sabe su señoría que eso

pero yo creo que en las intenciones de lo que usted plantea

hay bastante aproximación le habíamos ofrecido la posibilidad de un acuerdo yo creo que

hacia otros aspectos que no planteaba en su propuesta en su moción y entonces bueno pues ha querido hacerlo con otros elementos y

se ha quedado un poco descolgado veamos cómo está en este momento las cosas que propone mire sobre la primera sobre la conexión

implica técnicamente una congelación temporal de desarrollos informáticos hasta que se culminen los trabajos de adaptación por parte de la sociedad informática del gobierno

pero se está en un proceso y en un proceso que tiene su tiempo

culminará en el primer trimestre de dos mil veinte por lo tanto estamos sobre el objetivo que usted se plantea porque es el objetivo que ya estaba planteado por los departamentos afectados y por el propio gobierno en ese momento se podrá desarrollar el servicio que permita

según la solicitud de servicios que han presentado y la respuesta se ejecutará en dos fases no obstante en este momento está funcionando un piloto con una comisaría y se puede asumir por tanto que durante dos mil veinte la ertzaintza operará

y podrá gestionar los atestados telemáticamente sobre la segunda cosa que plantea

a la hora de favorecer la mejor capacitación de todo el personal profesional de los servicios de seguridad pública de euskadi los presupuestos dos mil veinte son una manifiesta expresión

apreciar el ingente esfuerzo formativo que en los últimos tiempos se viene desarrollando y que han obligado llevar a cabo transformaciones de todo tipo en el seno de la academia para mejor

de capacitación en breve el consejo rector de la academia

para el próximo año en el que la apuesta por incidir en la mejora de los procesos de investigación va a estar presente tanto en lo que se refiere a los programas de formación de agentes en la escala básica como en los cursos de especialización que se programan

asimismo se está como he dicho anteriormente en permanente colaboración con fiscalía y judicatura implicando a jueces y fiscales en esos procesos metodológicos y formativos y contando con su presencia y su labor docente en este sentido

no tiene otro objetivo que preparar a los y a las mejores profesionales

según las necesidades y la realidad de cada momento nos encontramos ante la renovación de toda la plantilla de la policía vasca ya hace treinta y siete años desde que comenzó la primera

y la formación ha ido cambiando como no puede ser de otra forma a lo largo de los años porque también ha ido cambiando

a los que nos enfrentamos en el campo de la seguridad y de la justicia en relación al curso de ingreso ya desde la veintisiete promoción se han integrado

con una duración de veintiuno horas de clase prácticas

para la recogida de denuncias sencillas con una herramienta informática propia de la ertzaintza en el caso de la especialización de investigación criminal ocurre lo mismo

todos los años desde la legislatura pasada así se estableció se está ejecutando durante todo el dos mil diecinueve y hasta mayo del dos mil veinte el curso para ciento sesenta plazas convocadas en dos mil dieciocho

de dos mil veinte respecto a la actualización jurídica en investigación criminal

si vamos a los cursos de actualización y perfeccionamiento en cursos realizados este año se encontrará con que

patrones de sangre básico de inteligencia taller de delitos de odio discriminación de personas desaparecidas y otros más

en la formación en dos mil veinte se pretende culminar ese proceso creo que estábamos bastante cerca del planteamiento que usted hacía lo precisábamos mejor porque había un aspecto como ya le he señalado que no era posible asumir y por eso creo que

en nuestra enmienda transaccional en realidad usted tiene la salida perfecta para no quedarse solo
que es apoyar la enmienda que hemos presentado eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak

decir que la sustanciación de la interpelación que da lugar a esta moción el señor ruiz de arbulo

como el incremento de los delitos en el dos mil dieciocho o el número de personas inculpadas

le dio una serie de datos objetivos bastante evidentes sobre la eficacia y eficiencia policial alguno lo ha mencionado usted

le mencionó en primer lugar la apuesta clara y decidida del departamento de seguridad

para la prevención y persecución de los delitos que se concreta en que uno de cada cuatro agentes está dedicado a investigación a funciones de policía judicial o inteligencia también le mencionó la tasa de resolución de los delitos estratégicos considerados así por todas las policías europeas por la alarma social que generan

en este año en estos once meses se ha resuelto el cien por ciento de los homicidios o asesinatos consumados un total de nueve en esta comunidad y la tasa de resolución de las agresiones sexuales

y finalmente nos manifestó que somos la comunidad de todo el estado que más diligencias practica

gracias al esfuerzo y eficacia policial por lo tanto el panorama no parece tan negativo y caótico como usted trataba de presentarlo quizás demasiado influenciado por alguna visión sindical dicho esto usted centra la moción de hoy sus propuestas para mejorar la eficacia

respecto a lo que denomina los aplicativos informáticos más concretamente lo referido a la remisión telemática de los atestados policiales y su incorporación al expediente judicial electrónico es cierto

del país vasco de dos mil dieciocho como mencionó y también se planteó verbalmente la comparecencia que tuvo lugar hace unas semanas en esta comisión eso sí de una forma razonable y prudente también el pasado lunes

destacó la necesidad de mejorar la tramitación de los procesos en concreto los proyectos de mejora del expediente judicial para lograr un auténtico expediente electrónico o digital que nos permita acabar definitivamente con el papel bestalde

eta gainerako euskal administrazioekin interkonektatuta dagoena también manifestó el señor ruiz de arbulo que es un aplicativo informático que es sencillísimo y barato lo que ocurre es que no les da la gana hacer funcionar un expediente electrónico

a la señora beltrán de heredia porque ellos justicia tienen los medios preparados para recibir este tipo de información y todo eso y dicho esto

que largo no obstante tal y como le aclaró la señora consejera

y de hecho como decía usted hoy aquí en este mismo lugar lo ha reconocido y en su moción lo reconoce implícitamente al instar a los dos departamentos al de seguridad y al de trabajo y justicia y parece también que es consciente de las dificultades técnicas de dicho proceso

los plazos no obstante como decía el señor prieto

recoge se ajusta a la situación actual de este tema y

lógicamente defendemos en este punto la enmienda presentada el punto primero

respecto a la petición de más y mejor formación el señor ruiz de arbulo decía que utilizaba dos fuentes la de los representantes sindicales luego matizó que era el sindicato mayoritario de la ertzaintza que pide que se mejore y amplíe la formación de los agentes y el mundo de la justicia más concretamente la fiscalía del tribunal superior de justicia del país vasco y también concluía

ikerketa kriminalean eta ikerketa talde desberdinak osatzen joan dira en esta materia de la formación hay que tener en cuenta que es a la academia vasca de policía y emergencias

entre otras funciones organizar y desarrollar la formación para la especialización y la formación continua de los miembros de la policía y como saben ustedes dentro de la academia el consejo rector es el que anualmente aprueba dicha organización de la formación y

decir que en este consejo rector hay dos representantes de los sindicatos

y fue la reunión de trece de diciembre de dos mil dieciocho donde se aprobó por unanimidad el último plan la memoria del dos mil dieciocho y el último plan de actividades de la academia para el dos mil diecinueve incluidos he dicho aprobado por unanimidad incluido los representantes de los dos sindicatos con mayor representatividad de la ertzaintza incluso

como pueden ver hay una extensa y completa formación que lógicamente puede ser ampliada y mejorada en este sentido es curioso cuando menos

en los medios de comunicación afirme que la formación está paralizada y abandonada

margen de influenciar y cambiar las cosas si lo estima necesario en el consejo rector de la academia simplemente se limitan a aprobar con unanimidad el plan anual de formación presentado sin hacer ninguna propuesta seria

hoy aquí pide más formación más aplicativos informáticos pero luego donde puede cambiar las cosas y conseguir lo que pide en presupuestos qué iniciativas han presentado en relación con el departamento de seguridad los últimos presupuestos acordados con ustedes fueron los del dos mil dieciocho si no recuerdo mal aquí en el dos mil dieciocho sus prioridades en materia de seguridad para mejorar la eficacia y eficiencia en la ertzaintza fueron concretamente dos quinientos mil euros para la renovación del parque móvil de miñones y veinticuatro mil euros

un convenio con la asociación stop accidentes ahora se están tramitando los presupuestos generales de esta comunidad para el año dos mil veinte me gustaría saber cuáles son las aportaciones para mejorar la eficacia y eficiencia de la ertzaintza que ha presentado el partido popular tengo gran interés

decía usted que lo que no hay que no hay medios humanos suficientes para atender a los ciudadanos y lo comparto y lo comparto porque

y gracias gracias al gobierno español liderado por el partido popular ya sé que la señora nerea llanos lo sabe muy bien con la cabeza fue la que retrasó

la renovación generacional de este cuerpo por lo tanto está bien que reconozca que hay pocos agentes pero mire dónde está la cosa

aludía que la fuente utilizada era lo que decía el mundo de la justicia en concreto la fiscal jefe del tribunal superior de justicia que compareció como decía en la comisión de trabajo y justicia hace unas semanas

yo estuve en esa comparecencia y creo que aquí hace una interpretación o hacía una interpretación parcial y partidista de lo manifestado por la fiscal jefe y entiéndame bien señor arbulo no es que lo manifestado por la fiscal jefe sea partidista sino que la interpretación que usted le da es parcial

precisamente para la formación tanto en la especialidad de investigación criminal

se cuenta con el mundo de la justicia con la judicatura y la fiscalía para que den formación específica a los agentes y respecto a la enmienda de totalidad de elkarrekin podemos pues del concepto de seguridad humana a la tierra han presentado una enmienda en la que en su primer punto insta a los dos departamentos seguridad y trabajo y justicia

y a los informes anuales delincuenciales son competencia exclusiva del departamento de seguridad y respecto a la formación pues bueno me imagino que como usted sabe

y habrán podido ver cuáles son los cursos organizados e impartidos por la academia y a quién van dirigidos por eso nos choca

y también que hace hincapié en unos tipos de delitos que no son precisamente estos ni los más numerosos ni tampoco los considerados estratégicos a nivel de policías europeas se investigan y hay que decirle que se investigan todos los hechos delictivos conocidos señora garcía

que pasan por la academia finalmente hace referencia a la memoria delincuencial que se presenta ante este parlamento atendiendo al requerimiento legal de la ley de ordenación del sistema de seguridad pública de euskadi y el tema de las estadísticas delictivas y los registros de las actividades policiales lo tratamos el otro día

en la que llegamos a un acuerdo unánime por tanto votaremos en contra también de su enmienda y apoyaremos la presentada

ere entonces nos encontramos con un debate sobre la eficacia de la investigación de la ertzaintza y para ello como digo el señor arbulo nos trae una opinión la de los sindicatos

y la señora beltran de heredia nos trae una opinión que es la de la ciudadanía

del trabajo sociológico que hace el sociómetro por la cual dice que todo va fantástico y que todo está bien cubierto y creo

serio de un debate digamos objetivo para abordar dos problemas

es decir cuántos delitos se denuncian y cuántos acaban no persiguiéndose y la trazabilidad es decir dónde está la gotera dónde se pierde la pista al delito o al delincuente en la investigación policial

en la fiscalía o en el juicio oral en sede judicial o dicho de otra manera se constata un problema que vengo denunciando desde hace años

que se hacen públicos por parte del departamento porque en definitiva pienso que muchas veces el departamento prefiere que hagamos estos discursos y estos debates sobre opiniones

en vez de sobre datos objetivos fidedignos en vez de sobre un buen diagnóstico global sobre los delitos sobre sus circunstancias y sobre su

intentar extraer recomendaciones intentar extraer conclusiones sobre

para mejorar o para emplearnos mejor en bajar esa tasa de delincuencia datuen inguruko arazo kroniko bat

ruiz de arbulo todo va mal en la investigación de delitos beltran de heredia y ahora

vamos a ver entonces qué medidas se están proponiendo para enfrentar esa situación digamos de divergencia en el análisis ruiz de arbulo dice que todo el problema de la ineficacia en la investigación se va a resolver con la firma

para que los atestados pasen inmediatamente a justicia para que se ahorre papel y me parece bien y ojalá se pero me parece en cierta manera también señor arbulo que son pocas alforjas para semejante viaje o para semejante acusación o para semejante denuncia que usted hacía por cierto

pero en sus propuestas en la parte dispositiva tampoco traía ninguna iniciativa para resolver esto si no es que usted que considera que es suficiente mejorar la burocracia

colas y la ciudadanía pueda tener mejor acceso a interponer denuncia en cualquier caso el pnv se autoimpone un plazo para hacer esto mismo en su enmienda lo trasladan dicen que

pero lo que pasa es que tampoco supone ningún compromiso nuevo porque es algo que la señora beltran de heredia también nos dijo en el debate de la interpelación concretamente dijo en relación a la inclusión telemática en los atestados policiales en la plataforma digital jusitiziabat

no entiendo muy bien si es de la plataforma batera el que hay que buscar la conectividad con jusitiziabat o es al revés de justiziabat que se tiene que trabajar la conectividad

al menos raro y me voy a explicar he mirado algo para entender por qué hay dos plataformas informáticas

y he conseguido una declaración de un responsable de ejie de la sociedad informática del gobierno vasco que el año pasado a mediados del dos mil dieciocho decía

de modernidad de integración de conectividad de versatilidad iba a ofrecer un servicio a toda la administración

porque batera no se traslada a la administración de justicia o dicho de otra manera

no se traslada al departamento de seguridad en este caso

como digo porque ambas plataformas han sido desarrolladas por la misma empresa que es

y he registrado algunas preguntas escritas para saber por qué la misma empresa privada que ha sido subcontratada por el servicio público

para cuestiones informáticas por qué hacen dos plataformas dos programas informáticos que son incompatibles entre sí

proceso de compatibilización que es muy complicado que es muy costoso que técnicamente es muy dificultoso no lo sé

dos plataformas por qué los plataformas y por qué incompatibles en la cuestión de mejorar la formación aun asumiendo que la señora consejera

que el mero seguir implementando programas formativos que ya existe en cualquier caso nos vamos abstener ante todas las iniciativas que ustedes traen porque

esperemos que se haga y vamos a evaluar cómo se ha hecho segundo tendremos que analizar los programas

que ustedes dicen se seguirán implementando y creo que la novedad va a ser el informe sobre los datos delincuenciales que solicitamos al departamento de seguridad y que cuando nos lo traigan y leyéndolo atentamente esperemos que traigan

gracias señora presidenta señorías yo no soy nada catastrofista al contrario he empezado la intervención diciendo que tenemos una fantástica policía

a que sus funciones se cumplan mejor a ustedes igual les parece positivo que siete de cada diez delitos que se denuncian ante la ertzaintza se queden

porque no se consigue sacar adelante esa investigación a mí no me parece un buen dato creo que esa es una situación en la que cabe una gran mejora y para eso simplemente hemos puesto dos cuestiones encima de la mesa no lo que diga el sindicato mayoritario de la ertzaintza

hablaba de la necesidad de mejorar la formación de los agentes porque lo dicen todos los representantes sindicales

los propios agentes que ellos exigen y piden una mejora en la formación no estoy diciendo que no se les forme digo simplemente

en la básica en la general de todos y en la específica porque como bien dice la señora consejera que es la que más sabe de este tema de todos los que estamos aquí que para eso

agentes ha recibido formación en investigación criminal de los que se dedican a investigación de los de inteligencia y de los de investigación

ha recibido investigación es porque hay tres de cada cuatro que no han recibido esa información

por lo tanto entiendo que no habrá que mejorarlo habrá que mejorarlo

y no tienen nada que ver con proponer medidas económicas del presupuesto porque eficacia y eficiencia es hacer con el mismo número de personas y con el mismo dinero mejorar los objetivos e incluso con menos personas y con menos dinero mejorar los objetivos que se persiguen si es que como le dije el otro día a la señora consejera el objetivo que se persigue es ese o

mejorar la estadística para dar una imagen pública esa es la realidad de nuestras comisarías hay que darles mejores instrumentos y ustedes

en nuestra propuesta pero yo no estoy de acuerdo con lo que proponen ustedes yo pido que en el año dos mil veinte se ponga en marcha el expediente electrónico se lo pido a la señora consejera de seguridad a la señora consejera de trabajo y justicia y al señor consejero

y ustedes dicen que se sigan dando pasos para

mire la primera vez que oí hablar del expediente electrónico en justicia

aquello arrancó hace veintitantos años hoy a la velocidad a la que el gobierno vasco da pasos como dicen ustedes señor zorrilla y señor prieto en su iniciativa ese expediente electrónico en justicia

al cien por ciento ha mejorado mucho pero también se han tomado casi treinta años en esa mejora lo que nosotros pedimos hoy en la iniciativa es que se haga en el dos mil veinte que cuesta mucho dinero yo pienso que no es mucho dinero que cuesta mucho dinero dótenlo ustedes en los presupuestos que saben y conocen

dónde está fallando el asunto porque si llevan años con ello y no lo han hecho todavía es que algo está fallando o igual como insinúa

es porque aquí hay otros intereses de empresas privadas a las que se les ha pedido que diseñen un sistema informático que no sea el más óptimo para seguir invirtiendo durante años en ese sistema informático esas son las cuestiones que nosotros hemos traído aquí si es ser catastrofista que siete de cada diez denuncias se quedan

de conseguir resolverlas seré catastrofista pero yo creo que simplemente es una petición de que se mejore la tarea profesional

profesionales que son los agentes de la ertzaintza y para eso necesitan medios

entre otras muchas cosas y eso es simplemente lo que hemos venido a pedir hoy aquí ustedes no lo quieren y por eso parece ser que van a votar en contra de la propuesta que les hemos hecho pero bueno para eso están en los parlamentos para que unos propongan una cosa y otros voten a favor o voten en contra yo ya les he explicado por qué voy a votar en contra

que los dos temas importantes en esta materia son la cifra negra y la trazabilidad y hablaba de

a mí sí me gustaría saber cuáles son las medidas propuestas por eh bildu porque no las hemos conocido todavía

ya sabemos porque también lo ha manifestado que las políticas públicas de seguridad no están dentro de sus prioridades y presupuestariamente que es donde se puede

también hemos visto año a año sus planteamientos y dentro de ellos no están ni la formación de los agentes porque han planteado

presupuesto de la academia que yo creo que es bastante peor que seguir dando la mejor formación posible que es lo que nosotros planteamos ni tampoco el dotar a la ertzaintza de medios materiales para hacer frente a las conductas delictivas y hacer aflorar esta cifra negra

respecto al señor ruiz de arbulo bueno catastrofista yo creo que él mismo con sus expresiones y algunas de ellas he mencionado he repetido yo antes en mi primera intervención se define

aquí yo lo que sí visto el rigor que ha tenido en algunas otras cosas no voy a tomarlo como palabra de ley lo que sí que es cierto es que los hechos delictivos

en cantidad sino también lo que cualitativamente incide en la sociedad

ni tampoco la respuesta penal es la misma y por lo tanto tampoco lo es la policial

en lo que le manifestó la señora consejera respecto a la tasa de resolución de los delitos estratégicos y creo que los datos aun siendo buenos sí deben servir de acicate para mejorar todavía más decía que

ha vuelto a incidir que no es cuestión de dinero pero la formación y los medios qué son la formación y los medios lo mismo que los quinientos mil euros para la renovación del parque móvil de miñones es necesario dinero

pues le preguntaba qué propuestas habían planteado para este próximo presupuesto

que es su objetivo con esta propuesta con esta moción pues bueno no me lo ha dicho usted

de otro pleno o de otra comisión que se celebrará próximamente pero sí que tenía curiosidad

que el grupo popular plantea reducir incluso aplicaciones informáticas del departamento de seguridad partidas de aplicaciones informáticas del departamento de seguridad para hacer una bolsa para hacer una bolsa que supuestamente debe resolver la mejora

de la ertzaintza en cuanto a la lucha contra el delito y esta bolsa

a los alumnos y alumnas de la veintiocho promoción los gastos que les genera el transporte eso va a mejorar la formación eso

los aplicativos informáticos usted cree sinceramente que sus propuestas van en la línea de mejorar la eficacia y eficiencia aquí de palabra sí pero cuando hay que trabajar y hacer propuestas concretas y serias pues ya vemos

decía también que tres que si uno de cada cuatro agentes está dedicado

eso supone que tres de cuatro no han recibido esa formación lo ha dicho usted se podrá

la formación en investigación criminal es transversal y la reciben todos los agentes desde que inician el curso básico otra cosa es la especialización por lo tanto ese silogismo

igual que decía que haya más formación y así si hay más formación bajará o se elevará la tasa

de hecho en la investigación sí que la formación

la calidad de la investigación la participación ciudadana la colaboración ciudadana y en ocasiones hasta la suerte también y finalizo con

su compañera la señora llanos decía lo siguiente como señalan desde instancias sindicales ya vemos que las instancias sindicales les hacen mucha llamada

pues mire señor ruiz de arbulo recientemente y se lo dijo la señora consejera hace escasamente dos semanas se han publicado

cuál es la percepción que la sociedad vasca tiene de la criminalidad y eficiencia con que nuestra policía se enfrenta a ella

cuando se les pregunta qué tres problemas o preocupaciones principales tienen en su vía diaria solo el cuatro por ciento de la ciudadanía solo con todo el respeto

la percepción general sobre la delincuencia y la inseguridad ciudadana se mantiene en los parámetros estables desde el año dos mil doce en el entorno del diez por ciento muy lejos

principal problema para el cincuenta y ocho por ciento de la población vasca por encima incluso del empleo

y finalmente voy terminando señora presidenta cuando a la ciudadanía se le pregunta sobre el funcionamiento de los servicios públicos de euskadi

tres de cada cuatro personas dice que funciona bien o muy bien y estos datos

un acicate para mejorar todavía más por lo tanto la evaluación y percepción de nuestra sociedad no se corresponde con la percepción y valoración del grupo popular quizás

y efectivamente traía la cuestión del sociómetro y cuál es la opinión

y bien bien por el departamento bien por la ertzaintza mal por el departamento mal por el departamento de vivienda por el departamento de sanidad que aparece golpeado sin escrúpulos por este sociómetro que salen muy mal parados y tal vez aquello lo que nos indicaría es precisamente que su gobierno lo que debería hacer es

para equilibrar un poco cuáles son los datos que uno u otro tienen porque me imagino que gobernar no son departamentos estancos en los cuales seguridad esta fantástica

porque si miramos en el sociómetro la percepción de la ciudadanía sobre cómo

de trece ítems con lo cual tiene nueve departamentos o servicios por delante que la ciudadanía considera que serían prioritarios para invertir recursos antes que invertirlos en seguridad y es lo que dice el sociómetro

me dice que mi actitud mis planteamientos mis preferencias etcétera y precisamente si de algo quiero huir es de ese debate y precisamente por eso traje

seguridad el que se haga un informe por parte del departamento el que se solicite a personas académicas a poder ser imparciales independientes

diagnósticos y así poder enfrentar efectivamente el problema de la cifra negra es decir cuántos delitos se denuncian y cuántos no acaban investigados y el problema de la trazabilidad es decir de la gotera por dónde queda entre el

fiscalía y justicia y precisamente porque quiero huir de un debate subjetivo en base a prioridades en base a preferencias

es la primera vez que los cinco grupos de esta cámara tienen una decisión en materia de seguridad adoptada por unanimidad

vamos a ir viendo nos dejamos muchos pelos en la gatera en aquel debate nos dejaremos más en el futuro pero en cualquier caso todo sea por los datos por mejorar la estadística delictiva en este país y por adoptar los recursos necesarios única y exclusivamente en base a esos y no a otras cuestiones
de índole subjetiva o de índole política eskerrik asko arzuaga jauna eztabaida

ruiz de arbulo cerio jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

porque vivimos en la era de la digitalización no cabe duda el cambio de paradigma en los diversos ámbitos de la vida en este sentido es indiscutible

de esa realidad tenemos nuevos modelos de relaciones laborales en concreto y a lo que esta cuestión respecta estamos inmersos en un proceso paulatino de digitalización de la subcontratación laboral esos nuevos modelos de negocios conocidos

han generado nuevas realidades nuevos modelos de relaciones laborales precarizando en muchos casos las condiciones y situación de las trabajadoras y trabajadores hasta el extremo siempre en beneficio de las ganancias empresariales en eso se basan las empresas de reparto en zonas urbanas del sector delibery

de comida aunque transportan cualquier otro tipo de producto generalmente de consumo rápido y generalmente lo hacen en pequeñas distancias

mensajeros y mensajeras con contratos autónomos

por las empresas que han diseñado y han desarrollado

al borde siempre de la ley y sobre los vacíos legales que deja el derecho laboral

moto en coche o incluso en transporte público y no tienen ni baja por enfermedad les corresponde

en estas condiciones este tipo de compañías pueden tener en cada ciudad todos los mensajeros y mensajeras que quiera de una forma barata y sin

absolutamente nada bueno de una única cosa que es la de ingresarse una cantidad de dinero por cada entrega que hacen estos riders

que las clases dominantes ponen los medios de producción y los y las trabajadoras como no tenemos nada estamos obligadas

de trabajo y es así como aparece la explotación de las personas quedándose el patrón con la plusvalía que se genera empresas como glovo dan otra vuelta de tuerca a la explotación y si el trabajador pusiera sus medios

en su propio medio de transporte con una app instalada en su propio dispositivo móvil y pagándose propia cuota de la seguridad social y sin ningún derecho a nada haciendo de esta manera realidad ese sueño de los tiburones empresariales del gran capital

y ya está aquí está entre nosotros y nosotras y todos y todas lo vemos por nuestras calles a diario y esto en un país digno no podemos permitirlo no podemos resignarnos y caer en es lo que hay ezin dugu herri duin batean

porque es cierto que el eje principal y central de la iniciativa se centra en aumentar las labores de inspección

esto sea lo más efectivo y en eso coincidiremos todos y todas pero este último punto también de la concienciación y de esa campaña específica dirigida a las personas jóvenes para advertirles de todas las consecuencias nocivas que traen este tipo de empresas entre nosotros y nosotras y en lo que respecta a la cohesión social nos parece que es también un punto importante

y es una realidad que junto además al hecho de disponer de una enorme capacidad para crear la demanda inducida sobre todo entre la juventud también está fijando poco a poco

de esta campaña es un hábito además de consumo que viene a agrandar la brecha salarial y que es perjudicial para la cohesión social porque perpetúa las condiciones

determinados colectivos y tiene una afección también directa como consumidores pero realmente estas empresas y los riders son solo la punta del iceberg

las calles de euskal herria pero aquí hay una cuestión de fondo una cuestión muy de fondo quién invertiría ciento cincuenta millónes de euros como en la última ronda de financiación en una empresa con pérdidas millónarias y que su futuro empieza

los tribunales quién haría una inversión semejante con unas pérdidas de cuarenta y siete millónes de euros hacer una inversión de ciento cincuenta millónes

la respuesta a esta pregunta es bastante sencilla son fondos de inversión privados algo que está constatado es una estrategia

estas empresas con este tipo de actuaciones lo que pretenden es destruir la figura de trabajador por cuenta ajena

y extenderlo poco a poco a todos los sectores de la economía paulatinamente por ello creemos que es hora de tomar medidas hacer propuestas y dar respuestas

directamente a todos y a todas nos afecta ya vamos algo tarde

instituciones como hoy lo estamos haciendo aquí es imprescindible pero al mismo tiempo hay que tomar medidas como ya han hecho en otros lugares de europa desgraciadamente todo hay que decirlo no contamos con todas las competencias para hacer frente a esta realidad cada vez más presente en nuestro país

eh bildu en su iniciativa originaria el tema de la seguridad social porque

que dependen del gobierno del estado por lo tanto no contamos con todas las competencias pero sí que podemos hacer mucho desde nuestras instituciones y desde nuestros gobiernos y hasta la fecha solo se está haciendo como he dicho desde la inspección de trabajo y es una cuestión que ya he puesto en valor y que creo

justo ponerlo en valor que no es poco pero no lo es todo por lo tanto hoy damos un paso un paso importante manifestando la oposición de la sociedad vasca a este tipo de empresas pero deberemos

decisiones estableciendo medidas haciendo uso de las herramientas que tenemos a nuestro alcance porque en definitiva lo que hay que hacer es

porque se vaya a aprobar la iniciativa transaccionada porque efectivamente

esta realidad que es una realidad preocupante que nos ha explicado el señor estarrona que trae la iniciativa original y que desde luego a nuestro grupo le preocupa y considera que las instituciones vascas que empezar a trabajar para acabar con este modelo y para evitar que este modelo se pueda instaurar en nuestra sociedad estamos ante

brutalmente explotador un modelo perverso y un modelo además fraudulento

deben esforzarse en erradicar de euskadi se trata de un modelo

que utilizan estas empresas amparándose o mejor dicho utilizando las nuevas tecnologías como aliadas para la explotación salvaje de trabajadoras y trabajadores ese es su objetivo concreto en nuestro caso la trampa utilizada por estas empresas para sortear y evitar los derechos de las y los trabajadores se hace a través de obligar a estos a hacerse autónomos y establecer un contrato mercantil con la empresa

de esta manera los trabajadores no pueden tener la protección y los derechos que les puedan corresponder en base al estatuto de los trabajadores o de los convenios colectivos correspondientes y sin embargo sabemos todas y todos que no son autónomos reales porque su actividad y su relación con la empresa es la de un trabajador

en mi opinión ni siquiera deberíamos hablar de falsos autónomos porque no se trata solo de que trabajen para una sola empresa

trabajador en las características de dirección organización del trabajo jornadas régimen sancionador obligaciones disfrazado eso sí a través de eufemismos sin embargo las y los trabajadores por el contrario carecen de todo tipo de derechos empezando por el de negociación colectiva

vacaciones o cualquier otro tipo de derecho las empresas beneficiarias ya se ha dicho también trasladan los costos de la producción a los trabajadores pero no trasladan los beneficios ni en forma de salario ni en forma de condiciones

son pura especulación sobre la fuerza del trabajo utilizando para ello las redes digitales y son además un fraude al conjunto de la sociedad

un fraude multimillónario a la seguridad social por lo tanto son un fraude a las y los trabajadores y son un fraude al conjunto de la sociedad

no es del todo nueva en el caso de euskadi se vienen utilizando fórmulas similares desde hace años en algunos sectores de manera bastante generalizada por ejemplo en el sector del transporte

pensamos que estamos en estos momentos ante una auténtica operación política una operación e ideológica que pretende utilizar a algunos sectores y además a la juventud como un auténtico banco de pruebas del capitalismo que viene no solo en el caso de euskadi pero también en el caso de euskadi estamos siendo banco de pruebas

que algunos laboratorios neoliberales vienen años elaborando y teorizando y que está puesta en práctica ayer en la comisión de empleo tuvimos una comparecencia de una profesora de la universidad del país vasco en relación a esta cuestión yo hablaba en mi intervención del sueño húmedo de los capitalistas y así es el sueño húmedo de los capitalistas más salvajes ya está aquí a través de este modelo este modelo es un banco de pruebas para dirigirnos al auténtico marco de relaciones laborales deseado y soñado por estos capitalistas

en que las relaciones laborales no existen porque no se reconoce la existencia de la clase trabajadora la operación pretende que asumamos que en estas empresas no hay trabajadores y empresarios y esto no es verdad siguen existiendo los trabajadores

para ellos individuos que establecen relaciones entre iguales y esto no es verdad es solo la manera de intentar acabar con los derechos de las y los trabajadores es el sueño de toda la vida del capitalista y del liberalismo económico

se ha pasado de la búsqueda de la individualización de las relaciones laborales para acabar con la fuerza de la clase trabajadora en la defensa de sus derechos a directamente pretender implantar un modelo sin relaciones laborales y sin ningún derecho por lo tanto para las trabajadores por lo tanto pensamos que se trata de una cuestión efectivamente de fondo no estamos abordando una cuestión concreta de que algunas empresas en nuestra comunidad autónoma estén incurriendo

para no respetar los derechos de las y los trabajadores estamos hablando de un auténtico modelo que se está implantando en algunos sectores concretos para posteriormente seguramente desenvolverse en otros de hecho ya lo está haciendo nosotros ayer de la comparecencia nos quedábamos con una cosa muy importante se decía inspección inspección inspección

en mi opinión una excelente intervención muy aclaratoria para todos los grupos y así lo expresaron además todos los grupos de la cámara

inspección inspección tenemos en la administración pública vasca tenemos

una herramienta fundamental para abordar esta cuestión una herramienta fundamental para erradicar este tipo de empresas este tipo de prácticas

por eso nosotros venimos también mucho tiempo diciendo que tenemos una inspección que no es suficiente para la realidad laboral que tenemos en nuestro país nos parece esta cuestión muy importante ayer también se entendía

un auténtico mapa de la explotación laboral en euskadi y uno de los puntos que recoge

el referido al consejo de relaciones laborales va por ahí y nos parece fundamental si hacemos el mapa de la explotación laboral

nos daremos cuenta que efectivamente no contamos con la inspección de trabajo suficiente pero contamos con una inspección de trabajo y se tiene que actuar

a hacer cosas y sobre todo de que este el debate en un lugar como este porque en las calles ya lo estaba

los colectivos ya se han organizado contra este modelo de explotación trabajadoras y trabajadores de estas empresas vienen hace tiempo organizándose con multitud de dificultades lógicamente por lo que ya se ha dicho las dificultades que tienen de organizarse sindicalmente en este tipo

de serlo ni de pertenecer a una clase social porque algunos

en el que se nos quiere hacer creer que no existen y por lo tanto las trabajadoras y los trabajadores ante esto también se organizarán y también lucharán contra ese modelo

en las instituciones y desde luego me parece fundamental tenemos que hacer nuestra parte tenemos que acompañar a las trabajadoras y trabajadores en sus dificultades para organizarse para acabar con este modelo perverso

para acabar con este modelo fraudulento perverso y para erradicarlo de nuestra comunidad autónoma nada más eskerrik asko

gracias presidenta de nuevo debatimos sobre

hoy pero ahora respecto de las medidas que es necesario adoptar a la precarización laboral y las repercusiones negativas y los hábitos de consumo creados y promovidos por la economía uberizada y ayer como ha señalado ya el señor hernández escuchamos en la comisión de empleo y políticas sociales la comparecencia de

y de trabajo social de la upv y nos expuso los resultados conseguidos en su tesis doctoral sobre la materia

que son muy diferentes de las hasta ahora conocidas derivadas de la nueva economía que han generado una precarización de las condiciones de trabajo siendo el colectivo más vulnerable y fundamentalmente afectado jóvenes inmigrantes

de larga duración en esta situación se encuentran las empresas de reparto en zonas urbanas del sector delibery como pueden ser la empresa deliveroo o glovo

mensajeros y mensajeras se les conoce como riders y se dedican al reparto fundamentalmente de comida aunque también pueden transportar cualquier otro tipo

ya que no todas las plataformas son iguales ni interactúan

lo que hace más compleja también la situación el pasado diecinueve de septiembre la sección cuarta de la sala de lo social del tribunal superior de justicia de madrid

en la que se rechazaba el recurso de suplicación que se había presentado contra la sentencia del tres de septiembre del dos mil dieciocho del juzgado de lo social de madrid y que había desestimado una demanda presentada contra glovo donde se solicitaba fuese considerado como trabajador por cuenta ajena una relación de falso autónomo económicamente dependiente

sobre el modelo laboral de las plataformas de reparto dado que esta sentencia unifica doctrina en esa instancia la sentencia declara improcedente el despido y declara la obligación de readmisión y su consideración como trabajador por cuenta ajena debiendo de contar con un contrato ordinario

sufrido con su moto mientras el trabajador realizaba un reparto voy a entrar un poco a desgranar esta sentencia porque es muy explicativa de la situación que estamos debatiendo hoy en este pleno el demandante tenía un contrato de prestación de servicios para la realización de recados pedidos y microtareas como trabajador autónomo

ya que había declarado que el setenta y cinco por ciento de sus ingresos provenían de la empresa glovo esos recados

previa reserva de una franja horaria y zona geográfica en la que quería trabajar

el móvil y recibía los pedidos recibió una cantidad económica por pedido así como una cantidad por kilómetros y tiempo de espera percibía unos

por pedido percibiendo el abono quincenalmente de la empresa

estaba satisfecho solo podía interrumpir su actividad durante dieciocho días hábiles al año consensuando ambas partes el periodo de disfrute y mientras realizaba el servicio estaba permanentemente localizado a través

donde se registraban los kilómetros realizados en el servicio la sentencia concluyó que sí existía dependencia y la actividad era retribuida y que debía ser considerado

económicamente dependiente como lo denomina la ley del estatuto del trabajador autónomo este es un ejemplo de esta nueva actividad en esta sentencia se señala la necesidad de contar con un marco

no existente esta situación ha hecho que el control de esta actividad esté recayendo fundamentalmente sobre la inspección de trabajo y los jueces de lo social

muy flexible y muy diferente hasta las hasta ahora conocidas y determinando el estatuto jurídico que tienen que serle aplicables esta actividad

recientemente en españa no contamos aún con esta normativa que puede acabar con los desequilibrios sociales existentes en este momento y que limite el poder otorgado a este tipo de empresas trasnacionales estamos ante una digitalización de la subcontratación laboral que deja fuera del ámbito laboral al personal afectado al que no se le aplica el estatuto de los trabajadores ni se efectúan

hasta la fecha existían sentencias en una cantidad equilibrada tanto a favor de que podían ser considerados trabajadores autónomos como a favor de que fueran considerados trabajadores aunque ahora se empiezan a unificar sentencias en favor de esta última consideración como acabo de indicar se han extendido por parte de la inspección de trabajo a nivel nacional actas de liquidación de cuotas a la seguridad social por valor de millónes de euros solo en barcelona se extendieron dichas actas de liquidación por valor de tres coma ocho millónes de euros por trescientos repartidores estamos hablando de cifras importantes y también tiene una repercusión fiscal

por el trabajador afectado de una retribución por los servicios muy inferior a la que percibirían otros trabajadores en otros sectores de actividad a nivel estatal

llevar a cabo una nueva regulación de esta actividad pero mientras esto se produce después de formar

aquí podemos adoptar medidas que puedan servir para paliar esta situación por eso quiero dar las gracias a los grupos parlamentarios que hemos firmado esta enmienda

un esfuerzo para poder consensuar y llevar a cabo esta enmienda transaccional que creo que es importante y en dicha enmienda transaccional

la oposición a esa situación que estamos planteando hoy aquí para que esos trabajadores sean

como una relación laboral de trabajadores por cuenta ajena pero también se insta a la inspección de trabajo como se ha indicado del gobierno vasco a seguir con la colaboración que está llevando a cabo con la inspección de trabajo estatal en esta materia porque obviamente se trata de actuaciones en materia de seguridad social y la coordinación entre ambas es importante porque se sigue manteniendo

de la inspección y en eso lo ha hecho muy bien el departamento de trabajo y justicia

en iniciar esas colaboraciones entre inspecciones para poder efectuar campañas de lucha contra el fraude que están dando importantes resultados y hay que seguir haciéndolo por eso lo recogemos en esta enmienda transaccional y además a que siga llevando a cabo esa colaboración esos acuerdos de colaboración que mantiene con las haciendas forales

que los adapte en el caso de que sea necesario en un futuro adaptarlos para conseguir los mejores resultados por otra parte también se pide al consejo de relaciones laborales

de su propia normativa la ley cuatro barra dos mil doce del consejo de relaciones laborales pueda llevar a cabo actuaciones para informar detalladamente sobre la uberización de la economía y estudios que realicen y definen el alcance

en euskadi que puedan aportar datos importantes y también como es importante la concienciación y el conocimiento de esta situación considerábamos que era

importante que apareciera una referencia a también a instar al departamento de turismo comercio y consumo a que continúe realizando las campañas sobre consumo

se realice también una campaña específica dirigida a los jóvenes para que conozcan los aspectos negativos de este tipo de actividad y todo esto además se ampara dentro de lo que nos marca y nos pide

dos mil treinta de naciones unidas que hace referencia a la producción y consumo

yo creo que son medidas importantes que nos van a poder también poner nuestros granitos de arena desde nuestra comunidad autónoma vasca para avanzar en el control de esta nueva realidad

y este cambio tiene unos concretos factores que no podemos perder de vista la digitalización es uno de ellos la capacidad de procesar guardar y comunicar la información

que aunque es anterior a este momento muy anterior a este momento en unión a la digitalización consigue un incremento exponencial de las tareas que se pueden automatizar y el tercero la plataformización

y es evidente que este cambio ha llegado para quedarse porque esos factores van a persistir la cuestión no es la aparición de estos factores que no son buenos o malos en sí de hecho yo creo que son buenos son evolución

un algoritmo no es malo en sí es una herramienta muy potente nada más y nada menos conozco una empresa que está utilizando

y están encantados tanto la empresa como los trabajadores

se utiliza solamente con el objetivo de incrementar la productividad seguro que alguna condición

es otra herramienta es otra herramienta tremendamente potente ayer una compañera ayer mismo me comentaba como una app de seguimiento médico de una enfermedad crónica había cambiado

y cómo había cambiado también es evidente las formas de trabajo de los profesionales sanitarios pero en algunos casos los que hoy tratamos

entre empresa y trabajador la conectividad podría mejorar las condiciones laborales

esta es la cuestión que debatimos hoy la imagen del cambio se han generado nuevas realidades nos dice en su justificación el señor estarrona y estoy de acuerdo normalmente ante una iniciativa ante la descripción que se hace en su justificación

a ese planteamiento suelo intentar poner en su justa medida esa descripción aun entendiendo que mi justa medida es un baremo claramente subjetivo

hoy no es el caso creo sinceramente que la realidad que usted nos traslada solo es la punta del iceberg como también han apuntado creo que afecta a muchos más sectores

no voy a enumerarlos y que tiene cantidad de impactos calidad de vida seguridad laboral económicos que también se han ido apuntando herramientas cuando estos factores estos cambios impactan de forma negativa en el ámbito de las condiciones laborales

a estos inadecuados cambios la esencial la herramienta básica esencial es el ordenamiento jurídico y cómo está el ordenamiento jurídico del estado en esta cuestión bueno pues si hiciesemos un dibujo tendríamos el mundo de la normativa laboral

ese mundo el mundo de los trabajadores por cuenta ajena y tendríamos el con el que en algunos aspectos de esa regulación somos tremendamente críticos

o por cuenta propia cuyas normas están diseminadas derecho civil derecho mercantil derecho administrativo sí es cierto que el estado hizo un intento en el año dos mil siete

fuimos críticos con aquella normativa pero también valoramos el intento de dar cuerpo

y entendemos que es un esfuerzo que había que hacer

sigue siendo un reto para el estado creemos firmemente en la necesidad de el desordenamiento jurídico del estado en esta materia primera necesidad la necesidad de modificar la normativa laboral de los trabajadores por cuenta ajena

una normativa de trabajadores autónomos coherentes también creemos importante la necesidad de influir en las directivas europeas sobre la materia aquí también se ha hecho comentario al respecto la influencia de las empresas trasnacionales

será uno de los retos de esta nueva legislatura en el estado veremos veremos el compromiso el comportamiento de todos los grupos parlamentarios en cortes generales en cualquier caso este es un reto a medio a largo plazo podríamos decir y en un ámbito

no es nuestro y entiendo que usted señor estarrona cuando registraba su iniciativa perseguía

tanto en el espacio como en el tiempo nosotros la señora sánchez y yo así lo entendíamos y presentamos una enmienda a la totalidad en cuatro puntos

encuadramiento laboral inspección inspección y me falta otra inspección eran dos inspecciones en nuestro caso

me suena a la comparecencia de ayer de la señora de la doctora andrea de vicente por cierto un agradecimiento a la doctora

por solicitarla esa comparecencia sirvió además de por sus interesantes contenidos creo que sirvió para centrar el debate de hoy hoy el debate de hoy la clave y ya se ha apuntado es la inspección

a las y a los trabajadores a darse de alta como autónomos cuando deberían ser trabajadores por cuenta ajena desde el primer momento vimos que estábamos cerca de lo que usted planteaba y que el objetivo era esencialmente compartido sí me gustaría subrayar un detalle porque no compartía del todo algunos detalles

también se subrayaron en la comparecencia de ayer referido y al señor

hernández esto le interesaba al empate técnico en las sentencias hasta hoy el empate técnico nos decía la señora de entiendo que la unanimidad judicial

en sentencias sobre casos individuales cuyo origen no ha estado en actuaciones de la inspección es decir creo que hay un patrón creo que no hay empate técnico creo que hay un patrón ir de la mano de la inspección por decir casos que tienen origen en las actuaciones de la inspección cuando se da ese elemento

se va en grupo se organizan los trabajadores en esos casos las sentencias son claramente en un sentido en el sentido de defender esas condiciones laborales

y esto podría plantearlo como una aportación no porque esto me hace pensar cómo se

la historia la historia nos demuestra que aunque la tecnología se nos presente en muchos casos como una amenaza intrínseca para el bienestar de las personas trabajadoras

cambios innovadores en la organización de los trabajadores tácticas estratégicas estrategias y métodos que

a aquel impacto al impacto de aquellos cambios hay que utilizar en beneficio de las buenas prácticas las nuevas tecnologías que están haciendo entrada en el entorno laboral ya existen experiencias en las que trabajadores precarizados por tecnologías abusivas las han aprovechado para conectarse

reclamar condiciones justas exponer sus reivindicaciones a la opinión pública etcétera

nació porque las relaciones laborales en el mercado de trabajo se articulaban en virtud de contratos civiles contratos societarios o mercantiles y esto provocaba una disfunción fruto de la cual surgió el contrato de trabajo

y aprovechemos la oportunidad hoy damos un buen impulso a mi modo de ver hacia esa oportunidad con el acuerdo que firmamos solo agradecerle al señor estarrona por traer la iniciativa por plantear la comparecencia de ayer y por su trabajo en orden a poder acordar ampliamente incluidos los colores dentro de su texto que algunos nos han gustado mucho aunque el naranja no es nuestro color preferido

pues llamaremos riders a los recadistas y a los mensajeros de toda la vida y nos quedamos todos más contentos y somos más modernos

al final la clave de esta propuesta que viene de parte de eh bildu pues se concreta en una cosa la inspección de trabajo digamos de estas profesiones

sobre todo cuando se hablaba de la uberización de la economía porque esto es en fin una parte muy pequeñita de eso

me referiré a eso a mí me sorprenden varias cosas una al final todos han dicho aquí el problema es la inspección pues bueno la inspección pero yo no entiendo y me van a permitir

que en la transacción que firman digan que hay y citan tres empresas con nombres y apellidos que dicen que

precarizan a los trabajadores a través de formas fraudulentas destinadas a evitar obligaciones empresariales en el ámbito laboral

cuando tendría que estar yendo corriendo a la fiscalía a denunciar a estas tres empresas

porque es que esto es un delito no es que se infrinjan los derechos laborales es que en la legislación española laboral también hay delitos laborales

y ustedes dicen que tres empresas hacen esto no sé qué hace usted sentada ahí y el lehendakari ahí en vez de ir corriendo a la fiscalía a denunciar que en euskadi hay tres empresas

no me lo explico como tampoco me explico en el punto segundo que la señora sánchez nos diga que el departamento lo ha hecho muy bien y salgan todos aquí pidiendo más inspección más inspección y más inspección

en qué quedamos porque ustedes lo que le instan a la inspección de trabajo del gobierno vasco es a que siga

en todos estos temas tercer punto que se haga un acuerdo del departamento con las diputaciones y

hace años pero a ver que

ayudando con ese convenio que ya existe hace años ayudando también a garantizar el cumplimiento por parte de las empresas de sus obligaciones fiscales

o de los riders porque las empresas evidentemente hacen sus declaraciones fiscales evidentemente también donde tienen el domicilio fiscal

de este tema es el gran problema de este tema pero como no estamos hablando al final de la uberización sino de los repartidores pues habrá que limitarse a hablar de los repartidores

porque que ustedes le pidan al consejo de relaciones laborales a informar detalladamente de la uberización de la economía y los nuevos modelos de relaciones creados a y realizar estudios que analicen y definan el alcance de este modelo

todos todos los sectores de la economía hoy en euskadi están afectados todos no hay ni uno que no esté afectado porque si no seríamos una economía tercermundista

que no lo somos claro qué es la uberización o qué se entiende por uberización

plataformas le llaman de economía colaborativa

que por cierto están muy de moda todo el mundo está favor se habla de los emprendedores

esos jóvenes ganan mucho dinero algunos de ellos

los linche sino que todo el mundo les anima a que creen nuevas verdad eh propone personas con otras particulares sin intermediarios

bienes y servicios cuáles están ofreciendo hoy pues a ver una casa una habitación un coche una plaza de garaje

aparcamientos en la calle servicios bancarios servicios eléctricos cuando a todo el mundo se le llena la boca hablando

una de las mejores fórmulas para hacerlo es que la energía que se genere por particulares se ponga a disposición mediante una app del sistema

supongo que no estamos en contra de esa uberización porque es que el sistema eléctrico también está uberizado el telefónico ni se lo voy a contar el señor aiartza ha hablado de los servicios médicos también están uberizados y podemos hablar hasta de los servicios jurídicos también todo está uberizado entendiendo por uberizado

pues los consumidores los consumidores que son los reyes del mambo en este caso los consumidores deciden si utilizan esa plataforma

los consumidores deciden si por lo mismo están dispuestos a pagar más o prefieren pagar menos

no son los fondos decía los fondos capitalistas no sé qué decía el señor hernández creo que era

no sé si usted está a favor o en contra de los pensionistas pero claro los pensionistas hoy estaban ahí fuera verdad quieren más pensiones

es que los americanos también quieren más pensiones y cobrar sus pensiones y quieren más claro quieren que sus fondos donde están ahí

todo el mundo quiere cobrar una pensión mayor y yo

no es que haya venido vino ya hace tiempo por supuesto se va a quedar lo de poner puertas al campo pues en fin el que quiera intentarlo que lo intente que lo intente pero es evidente

la calidad de vida de casi todo el mundo y tiene aspectos que pueden ser negativos uno no se ha hablado aquí pero probablemente puede ser el que más riesgo tenga

lo que se puede producir es un monopolio acabar con la competencia

pero al final también lo sufrirán los consumidores que han dado lugar a que se produzca ese monopolio y es evidente

en fin estar preparados para que esas cosas los efectos negativos de la modernización de la economía o digitalización como ustedes quieran llamarlo no se produzcan

no sé cuánto más tiempo seguiremos sin gobierno pero eso no es una responsabilidad de momento de momento nuestra

y lo que sí tenemos que tener claro como también decía el señor aiartza es cómo se aplican

cómo lo regulamos y cómo garantizamos los derechos de todo el mundo de los consumidores y de los trabajadores y eso con perdón pues aquí no viene pero el estudio está muy bien que el consejo de relaciones laborales lo estudie y nos diga

los agricultores se quejaban de la uberización de la agricultura en alguna página web

punto seis de su transacción el parlamento vasco hace un llamamiento a instituciones y administraciones a que dentro de sus competencias adopte las medidas pertinentes para garantizar los derechos de libertad sindical negociación colectiva no lo hacen

las diputaciones no lo hacen los ayuntamientos vascos no lo hacen hay que instarles a que garanticen estos derechos están en peligro hoy

esto es lo que dicen ustedes hombre y luego lo de la campaña de consumo responsable pues está muy bien

pero aquí estamos hablando del consumo responsable o de cómo me llega el producto a casa

compro o lo que todos compramos porque la campaña de consumo responsable qué es decirle de los aspectos negativos de qué

de las plataformas digitales que no los utilicen los jóvenes que son malas que

en fin a mí me parece muy bien que se hagan campañas de consumo responsable pero que tiene que ver eso con lo que estamos hablando o ahora resulta

yo pensaba que eso era el producto eh era el producto y que ecológicamente fuera más sostenido yo en cualquier caso

cuando ustedes nos dicen que hay empresas piratas en el país vasco y no las denuncian en el juzgado de guardia pues nosotros nos abstendremos

usted señor damborenea lo primero que hace es confundir la uberización de la economía frente a la de digitalización y los retos que tenemos en la era digital en la que vivimos actualmente eso

la digitalización y así tiene que ser pero no se puede hacer uso de esa digitalización ni de esa uberización de la economía de manera fraudulenta

a costa de la precarización de las personas trabajadoras y claro que existe ese acuerdo entre las diputaciones y la inspección de trabajo a día de hoy pero si se tomara la molestia de hablar con alguno de los técnicos que día a día tienen que acometer y tienen que trabajar sobre

algo para poder actualizar y adecuar esos protocolos y esos convenios firmados para poder dar respuesta de manera más garante a las nuevas situaciones generadas tras la bueno la digitalización de la economía en muchos

que solo atendía a una pequeña parte de lo que es la uberización de la economía no se preocupe en febrero nosotros y nosotras estaremos encantados de discutir la que usted traiga
de manera más amplia y que afecte al resto de sectores de la uberización económica eskerrik asko estarrona jauna

para un par de comentarios nuestro grupo desde luego también está de acuerdo que

sino el cómo algunos están utilizando las nuevas tecnologías para aumentar la explotación de las y los trabajadores de hecho por eso el principal problema

sino el fraude que utilizan a través de la figura del autónomo para lo que son trabajadoras y trabajadores realmente

y no es tan fácil ir a denunciarlas y a mí me parecería estupendo que la fiscalía actuara cuando se tienen pruebas pero usted sabe también que el camino de los tribunales no es tan

no están sencillo a nosotros nos parece que el debate que hemos tenido hoy

que los demás no saben muy bien de qué hemos estado hablando creo que los demás

porque creo que aquí todos sabemos de algunas de estas empresas vemos a los chavales y a las chavalas en la calle

es el ejemplo más digamos más visual efectivamente esto está en todos los sectores pero ese es el ejemplo más visual

de aquí para allí y a ver quién me dice que ese es un autónomo

que está relacionado en igualdad con la empresa me da igual como se llame glovo deliveroo lo que sea y no es un trabajador explotado y súper explotado eso lo sabemos todas y todos en este parlamento y lo sabe todo el mundo en la calle por lo tanto a mí me parece que la iniciativa y la transacción

puede hacer mucho en este sentido y ayer vimos también en la en la comisión cómo las actuaciones yo coincido también con lo que ha dicho la señora sánchez

fundamentales para las decisiones de los tribunales por eso necesitamos una inspección de trabajo mucho más potente que la que tenemos creo que la iniciativa

ni critica la actuación de inspección de trabajo me parece que la iniciativa lo que dice es

que haga y que vaya en ese sentido es lo que dice la

punto porque estábamos todos prácticamente de acuerdo pero creo que era importante salir para matizar

señor damborenea no estamos hablando de la realización de un delito no se confunda estamos hablando de un mal encuadramiento de trabajadores

en el régimen general de la seguridad social como trabajadores por cuenta ajena la unificación de sentencias le he dicho yo en mi intervención se ha empezado producir en septiembre de este año

que se han empezado a producir hace dos meses y es bueno empezamos a tener esa unificación de sentencias para unificar los criterios de actuación y no digo que usted no nos hayan entendido porque señor damborenea usted es muy visto y nos entiende perfectamente pero no nos ha escuchado

no nos ha escuchado nada de lo que hemos dicho porque esta es una nueva realidad y las soluciones se están cambiando ante una falta de una

ante una falta de esa normativa específica todavía en españa los cambios se han producido de la mano de las actuaciones de la inspección

que están dictando los jueces y eso es bueno y por eso estamos incidiendo en la inspección de trabajo no es que la inspección no haya hecho nada todos los que estamos aquí estamos diciendo

caso la actuación de la inspección de trabajo está siendo fundamental porque gracias a esa actuación se ha producido el cambio jurisprudencial

en esta situación que hoy hemos expuesto aquí y yo lo que he dicho en mi intervención también es que el departamento de trabajo lo ha hecho muy bien y lo vuelva a afirmar porque lo ha hecho muy bien porque hace dos años fuimos los pioneros

de coordinarnos entre las inspecciones a nivel estatal y a nivel de la comunidad autónoma

un año antes la empezamos aquí ustedes estaban en el gobierno y no lo hicieron tuvo que llegar pedro sánchez e iniciar esa campaña también a nivel nacional y coordinarlo aquí

para sacar los máximos resultados y ahí hemos sido nosotros por delante y lo que se hace bien es de justicia decirlo que se hace bien y reconocerlo

de la situación de fraude que se produce en un determinado sector y nadie ha dicho aquí que las redes

sean malas etcétera etcétera no yo creo que las redes tienen sus cosas positivas

y la economía digitalizada tiene también sus cosas negativas

pero que lo negativo que va surgiendo hay que intentar ponerle coto para que no se produzca una precarización de un determinado

que tenga reconocidos menos derechos que el resto de trabajadores

en otros sectores de actividad por tanto yo creo que eso

de todo el mundo y por eso yo creo que hoy hemos hecho un buen trabajo los grupos que hemos hecho el esfuerzo

al grupo nacionalista vasco porque entre los cuatro hemos conseguido entendernos llegar a un acuerdo para poder ir dando más pasos en el control del fraude

muchas gracias señora presidenta señor estarrona me dice que no se puede hacer de manera fraudulenta pues claro ahí estamos todos de acuerdo

o la fiscalía dependiendo si es sanción laboral o si es sanción penal ahí estamos todos de acuerdo

pero como siempre como toda la vida ahora lo que no me puede decir usted aquí es que no es tan fácil denunciar sin pruebas pues usted ha afirmado que son unas empresas piratas no sé qué pruebas tenía

que son piratas y lo firman todos sin pruebas y quiere que yo se lo apruebe oiga no

todo tiene todo tiene un límite usted me habla de chavales y chavalas que andan claro todos lo vemos mire cuando se yanquiza todo

cuando se importa todo se importa también el modelo yanqui de los jóvenes que estudian y trabajan y se pagan sus estudios y tal cosa que aquí evidentemente

no ocurre y eso es lo que está pasando y como no se regula y como aquí no se regula

por nadie y competencias tienen varios en esta materia

señora sánchez me dice que no es delito si no es delito a qué viene decir que son piratas esas empresas claro si no es delito dice no es un mal encuadramiento de trabajadores bueno ya veremos cuando se resuelva definitivamente en los juzgados

qué es lo que es o deja de ser pero en cualquier caso para no ser delito

que esas empresas actúan de manera fraudulenta con la seguridad social y con trabajo eso sí es un delito

y me dice el departamento lo ha hecho muy bien oiga yo no le he dicho que lo ha hecho muy mal

porque inspecciona poco porque si no no le diría que inspeccione más por qué le dice que inspeccione más porque inspecciona poco